aurrean acostumbro a llamar la atención y a abundar en la idea de que esta ley en ninguna circunstancia es una ley cualquiera sino que es una ley que se proyecta al resto de las materias sectoriales competencia del gobierno vasco

del año veintiuno pero en esta ocasión además no es una ley cualquiera para un ejercicio cualquiera

de un año cualquiera es un ejercicio que hemos llamado de inicio de recuperación económica y mejora del bienestar general de esfuerzo económico endógeno

y de esfuerzo exógeno esperemos que insólito sobre todo en materia de fondos europeos y de afrontar un año incierto en lo sanitario y social con bases presupuestarias sólidas y realistas y con políticas públicas capaces

en solitario ha hecho un ejercicio de diálogo y en algún caso negociación con los grupos políticos

para que aportaran sus posiciones al proyecto en un intento de ensanchar los consensos que la realidad socioeconómica aconsejaba en el momento presente

no ha sido posible cerrar unos mínimos consensos en las cuentas públicas de este año con ningún grupo parlamentario y el gobierno en general y este consejero en particular lamentamos que haya sido así ya que era un buen momento para afrontar

un año que se antoja difícil en lo sanitario y en lo social izandako eta egon ez diren negoziazioak

el proyecto de presupuesto generales de euskadi para el año veintiuno asciende

y el presupuesto operativo es decir el disponible para gasto en políticas públicas aislando los activos financieros es setecientos setenta millónes de euros mayor

un siete coma uno por ciento más que el del año pasado lo he repetido en varias ocasiones con motivo de la presentación de los presupuestos generales de euskadi estos van a ser unos presupuestos sin recortes en las políticas públicas y lejos de la austeridad este presupuesto es una mirada valiente a nuestro futuro el camino para la reconstrucción social

lo afrontamos con fuerza y con confianza aurrekontu horiek

munduko ekonomia guztiak ere bizi dituen agertokia la pandemia ha afectado tanto a los países desarrollados como a los emergentes la gran mayoría de ellos redujo su pib de forma acusada en el año veinte

dos coma tres por ciento con un avance en el cuarto trimestre del seis coma cinco por ciento

en estos países desarrollados en el resto de los países desarrollados los descensos del pib van en el año dos mil veinte desde el cinco por ciento que se atribuye a alemania al once coma uno por ciento de españa

el nueve por ciento de francia el diez por ciento de reino unido los estados unidos que optaron por no restringir la economía a costa

anotaron una tasa de descenso del tres coma cuatro por ciento el pasado año y japón del cinco coma uno por ciento en estas cifras hay que situar la caída del nueve coma cuatro por ciento de la economía vasca

como avance el eustat a partir de este nivel el crecimiento esperado para el año veintiuno es del ocho coma seis por ciento por tanto no se va a recuperar este año todo lo perdido el pasado año ni en euskadi ni en las economías del entorno

indica un impulso del tres coma cinco por ciento para alemania cinco coma cinco para francia tres por ciento para italia cuatro coma cinco para el reino unido y cinco coma nueve

bultzakadarengandik en lo referente a euskadi

de los agregados de la demanda interna tanto el consumo privado un ocho coma siete como especialmente a la inversión pública un nueve coma cuatro por ciento pero también se anticipa una pequeña aportación positiva del sector exterior ya que las exportaciones crecerán por encima de las importaciones

del nueve coma siete por ciento anual el empleo se verá así beneficiado por el repunte de la actividad económica y en términos de personas ocupadas la creación de empleo la estimamos en

de forma significativa el número de personas que van a estar

los objetivos de estabilidad presupuestaria parece que en dos mil veintiuno

sea del dos coma dos por ciento objetivo que por un lado es una tasa de referencia y por otro contrasta con el ejercicio anterior donde se presentó un proyecto

no habrá de ser superior a la tasa de referencia del dieciséis coma nueve por ciento del producto interior bruto

de presupuestos para el año dos mil veintiuno alcanza los setecientos sesenta y ocho millónes de euros cincuenta y tres coma cuatro millónes de euros más que en el año dos mil veinte

y mejorar las políticas sociales y potenciar el desarrollo económico y el empleo así el setenta y siete coma ocho por ciento de este proyecto

sociales asimismo el ejecutivo vasco sigue apostando por la inversión pública que en el año dos mil veintiuno sin contar la y vasca ni la variante sur ferroviaria superará los novecientos cincuenta y cinco millónes de euros con un incremento del seis coma cuatro por ciento

y políticas públicas pero sí me voy a detener en algunas cuestiones concretas como les decía nos encontramos ante un presupuesto marcado por la pandemia razón por la cual incluye este presupuesto un programa covid dotado con quinientos cuarenta y dos millónes de euros distribuidos en los distintos departamentos

a su vez el proyecto de presupuestos recoge una apuesta firme y clara

en distintos departamentos con una inversión cercana a los quinientos treinta y seis millónes de euros lo que supone un incremento del nueve coma siete por ciento

este es un presupuesto de tránsito a la normalidad el gobierno vasco más que nunca sigue siendo fiel a sus compromisos de garantizar y mejorar las políticas sociales y potenciar

así y como ya se ha mencionado antes el setenta y siete coma ocho por ciento de este proyecto corresponde a políticas sociales de nuevo casi ocho de cada diez euros se destinan a salud educación empleo y políticas sociales

doscientos treinta y seis coma seis millónes más que en el año dos mil veinte un seis por ciento más

que experimenta un crecimiento también de doscientos dieciséis millónes de euros hezkuntza sailak hiru

y un incremento de treinta y siete coma tres millónes en términos absolutos seguridad manejará un presupuesto cercano a los seiscientos noventa y dos millónes

seiscientos cincuenta y cuatro millónes de euros tiene un incremento del nueve coma cuatro por ciento a su vez las políticas gestionadas por planificación territorial vivienda y transportes cuentan con cerca de quinientos siete millónes de euros berdintasun

presenta un presupuesto de ciento veintinueve coma cuatro millónes de euros para el año dos mil veintiuno

y la digitalización que se acercan a los sesenta millónes de euros en el presupuesto en el departamento de economía y hacienda gestionaremos un presupuesto de ochenta y siete coma tres millónes de euros con un incremento de treinta y dos coma cuatro millónes

de los costes de las líneas de financiación para las empresas pyme y autónomos

turismo comercio y consumo incrementa su presupuesto hasta los cuarenta y siete coma dos millónes

apustua egiten duena por lo que respeta al texto articulado del proyecto de ley de presupuestos generales para el ejercicio veintiuno

artículos doce disposiciones adicionales y siete disposiciones finales así como cuatro anexos que lo complementan en el título uno como novedad por primera vez se incluye en los presupuestos del ente público de derecho privado

el uno de junio del año veinte sin embargo no se incorporan los presupuestos de las sociedades públicas

que se encuentran en proceso de extinción tampoco se incluyen los presupuestos de las sociedades públicas eusko irratia

sa que han quedado extinguidas por su absorción por la sociedad pública

e i te be media sau por último también se incluye en los presupuestos de la sociedad pública

cuya creación se autorizaba a finales del año veinte batgarren tituluaren barruan gainera

eragiketetara ere sabemos que nos movemos en un ejercicio en el que las reglas de estabilidad presupuestaria básicamente el límite del

referentes pero sí les puedo anunciar que si tenemos que llegar en el ejercicio veintiuno a los límites que nos hemos marcado con materia de avales y endeudamiento fijados en la comisión mixta de concierto económico y que se recogen en el articulado de la ley o incluso ir más allá lo haremos sin que nos tiemble el pulso tal y como lo hemos hecho en el año

legislativos que sean el título segundo contempla en relación con el contenido de los presupuestos diferentes disposiciones

así en el capítulo tres del título se ocupa el régimen de retribuciones y haberes pasivos a este respecto con carácter general para todo el personal al servicio del sector público se prevé un incremento como máximo

con respecto a las retribuciones consolidadas en el año dos mil veinte incluidas las de carácter diferido

no se prevé el incremento de las aportaciones al sistema de previsión social por las entidades del sector público de la comunidad autónoma de euskadi y como ya adelante en mi comparecencia anterior esta decisión

por no encontrar cobertura legal directa para proceder a un incremento en estas partidas toda vez que el imperativo legal básico dificulta esta solución incremental

del ejercicio hubiera posibilidades de acometer aportaciones incrementales el gobierno

todo ello lógicamente sin entrar en otras valoraciones en materia de negociación colectiva berrikuntza garrantzitsu gisa

que el estado recibirá a través de esta iniciativa por tanto los recursos procedentes de europa

incrementados sustancialmente en los próximos ejercicios aunque de momento se desconoce en qué cuantía y en qué ámbito temporal repito

a falta de la concreción jurídica por las instituciones europeas de la puesta en marcha de algunos de estos mecanismos extraordinarios de financiación

como de la especificación del por el estado de los requisitos y condiciones para la gestión de los fondos y el papel de las comunidades en dicha gestión resulta oportuno

un conjunto de disposiciones que faciliten su incorporación a nuestros presupuestos así como la tramitación administrativa de las actuaciones y proyectos que financien

a cuentagotas vamos conociendo cada vez más sobre la revolución y vamos conociendo el modelo de gobernanza que el estado pretende utilizar

es conocido que hemos sido críticos con su contenido y con el modo en que se ha diseñado la conferencia sectorial que coordina las acciones que desarrollan para la entrada

y esperamos una cierta reconducción dado que nuestra ejecución presupuestaria y su eficacia dependen de ello hay pues bastante incertidumbre

que el gobierno vasco ha propuesto al gobierno de españa se basa en las propias directrices que europa está marcando a los estados de cara a optimizar la absorción de los recursos europeos procedentes tanto de los fondos estructurales

esta misma semana en los encuentros anuales entre la comisión europea y el gobierno de españa europa ha demandado la necesidad de coordinar los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia con los fondos feder en el periodo veintiuno veintisiete dadas las grandes similitudes existentes entre las diez palancas

españa puede y los cinco objetivos políticos del feder para el periodo veintiuno veintisiete

que propone euskadi pero ahora bendecida o avalada por europa en particular la comisión ha preguntado por las medidas que se van a adoptar para asegurar la complementariedad entre el mrr y el feder en cuanto a los criterios de selección la priorización y la gobernanza

edo behin betiko onartzean badira verán igualmente una identificación separada

ya que se contempla que el departamento de economía y hacienda pueda crear un programa multidepartamental con la clasificación orgánica y económica que determine

y que incorpore los nuevos créditos financiados con cargo a las transferencias y aportaciones de la administración del estado o de la unión europea

a la ejecución presupuestaria y justificación de los gastos vinculados a estas actuaciones y proyectos previendo asimismo

tanto para la formalización de los instrumentos jurídicos como para la gestión

gauzatze maila eta xede espezifikoa en relación a los ingresos el título tercero del proyecto de ley además de las aportaciones de las diputaciones forales acordadas en el seno del consejo vasco de finanzas

se ha considerado oportuno no incrementar la cuantía de las tasas

de la cuantía fija que estaba establecida con excepción de aquellas tasas que son objeto de actualización especifica en la disposición final primera de esta norma

no estructurada establecen determinadas especificidades respecto al régimen general de ejecución presupuestaria entre dichas disposiciones se incluye el incremento de la cuantía de la renta de garantía de ingresos en un porcentaje del uno coma ocho por ciento

el establecimiento de una cuantía de fija de doscientos cincuenta euros mensuales para la prestación complementaria de vivienda

al gobierno para regular y disponer cuando sea necesario en relación a los procesos de reorganización administrativa del sector público de la comunidad autónoma de euskadi

para la realización de una convocatoria extraordinaria de concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo de servicios de investigación y de apoyo a la docencia xedapen

erantzuteko el proyecto de ley se contempla con siete disposiciones finales que modifican determinadas normas legales para mejorar su operatividad tales como el texto refundido de la ley de tasas y precios públicos de la administración de la comunidad autónoma de euskadi

uno barra dos mil seis de veintitrés de julio de aguas en relación con la regulación del canon de agua

aprobado por decreto legislativo uno barra noventa y siete de once de noviembre el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre régimen presupuestario de euskadi

nagusiak el pasado veintiuno de diciembre y con motivo de la presentación del proyecto de presupuestos en la comisión hice una reflexión a modo de conclusión

con el fin de sondear la posibilidad de aunar voluntades en relación a la aprobación parlamentaria de las cuentas de este año y a ello me referiré a continuación para concluir

absolutamente determinante si entre todos y todas somos capaces este año de poner bases sólidas para un empuje

con los medios que tenemos y con los ingresos que pueden venir es seguro que nos irá mejor baina osasun ezegonkortasuna

que avanzan y no retroceden implementa iniciativas novedosas y eficaces pero como también dije y ahora mantengo el presupuesto anual no es un documento perfecto y siempre es susceptible de acoger mejoras

este gobierno no necesita apoyos especiales para su aprobación tampoco ha renunciado a buscar nuevos apoyos con el fin de enviar un mensaje social de mayor consenso

que será un año especial desde el gasto público lamentablemente no ha sido posible sumar nuevos apoyos aunque fueran parciales el proyecto planteado por el gobierno

soy consciente de que el presupuesto y su aprobación son actos eminentemente políticos

a exigencias directamente políticas a veces contradictorias con los intereses gubernamentales no resulta realista y no demuestra predisposición ni utilidad social

diferentes según los casos así como en los casos del grupo mixto

directa y sin retorno al anunciar ambos grupos casi de inmediato enmiendas de totalidad

con grupos como eh bildu o elkarrekin podemos en relación al grupo mixto y al grupo popular ciudadanos

que en nada participamos de su opinión sobre porque ni son unos presupuestos nacionalistas ni son unos presupuestos falsos

ni donde el exceso de lo público frente a lo privado toma de naturaleza son puntos de partida antagónicos para al menos el ejercicio veintiuno

única reunión con eh bildu ya que se planteó en términos de necesidad

de cuentas anuales en opinión del grupo mencionado se debía de situar en una posición completamente vicaria respecto

la remisión de una propuesta integral de seis páginas que llegó

no hubo segunda reunión ya que fue el propio gobierno el que apreció

de imposible aceptación un modelo negociador excesivamente pretencioso maximalista e inoportuno lejos de pretender ensanchar consensos en torno

de un hipotético acompañamiento de eh bildu a las cuentas del año veintiuno

pero nunca a condicionar las políticas públicas de quien gobierna con suficiencia numérica para aprobar en solitario el proyecto el epítome de esta concepción era la rupturista propuesta gestora de los fondos europeos donde se proponía hacer una defensa conjunta en madrid

y dar una respuesta conjunta en bruselas frente a medidas restrictivas y posibles cribados de proyectos en esas instancias

me pregunto si la acusación de bildu al gobierno en el momento de presentar su enmienda de totalidad al texto presupuestario de querer excluir a la coalición de las negociaciones

no será al revés esto es no será que como

no está dispuesta a pactar nada con este gobierno precisamente

elkar ulertu ahal izango dugu veremos si una actitud de acoso y derribo presupuestario o de máxima exigencia que viene a ser lo mismo no exigido por la coacción en otras latitudes donde su incidencia puede ser más decisiva

y ello porque este departamento va a querer incorporar nuevos apoyos al presupuesto también

y lo anuncio desde ahora las negociaciones del departamento con el grupo elkarrekin podemos voy terminando señora presidenta tampoco fructificaron pero se saldaron

con transparencia y creemos entender con conciencia de la situación

de elkarrekin podemos la última de las propuestas del gobierno donde la inclusión

no muy alejadas en muchos casos de acuerdos alcanzados en vivienda y fiscalidad por la coalición elkarrekin podemos en vitoria gasteiz con el gobierno municipal

podían unidos a la influencia de más de noventa millónes de euros en el margen presupuestario de este ejercicio haber sido mejor acogidos por el grupo

del gobierno como también lo es el hecho de que la interrupción de la negociaciones en este punto

en el seno de elkarrekin podemos de un exceso de responsabilidad institucional un cierto miedo al compromiso que resultaba este primer año

en todo caso con elkarrekin podemos se entabló un cierto espacio negociador

en este ejercicio pero en un marco de confianza y lealtad esperemos que se pueda consolidar con voluntad y realismo el próximo o próximos años lógicamente

entendiendo las lógicas posiciones políticas de todos y cada uno de ellos termino ya y lo hago volviendo a la primera parte de mi presentación esto es

como sabrán esta misma semana se han hecho públicos por las tres diputaciones forales los datos de recaudación correspondientes al año dos mil veinte una vez cerrado el ejercicio

antes del próximo quince de febrero pero puedo adelantarles que si bien se confirma la caída interanual de recaudación

vasco de finanzas públicas de octubre esta no ha sido de la intensidad que se esperaba esta ha caído un nueve coma ocho por ciento

del trece coma tres por ciento amaitu mesedez oraintxe bertan eskerrik asko

que nos hacen afrontar este ejercicio de manera sensiblemente diferente con seguramente mayor capacidad de afrontar nuevas iniciativas siempre desde la prudencia

con todas nuestras capacidades económicas a lo que se vaya derivando de la evolución de la pandemia sus consecuencias económicos

gracias señora presidenta buenos días lehendakari consejeros señoras y señores parlamentarios no voy a ahondar en cifras y datos porque el tiempo de que dispongo no me lo permite y voy a hacer una lectura global de los presupuestos la economía es el fundamento sobre el que pivota nuestro presente y nuestro futuro la responsabilidad de hacer unas cuentas realistas y coherentes con el panorama actual supone afirmar con rotundidad y creo que en eso estamos todos de acuerdo

en el verano de si salvaremos o no la campaña y si la pandemia terminará en el dos mil veintiuno o quizás en el dos mil veinticuatro no lo sabemos y no sabiendo esto lo que no se sostienen son las previsiones sobre las que se apoyan estos presupuestos nos endeudados en base a unas previsiones carentes de valor

no cabe duda de que la administración debe acudir a la deuda para poder superar este bache interminable pero no es de justicia pedir también que antes se ajuste el cinturón se imaginan una familia que pase de tener a todos sus miembros trabajando a de repente tenerlos en paro

como hacía todos los años sin saber cuándo volverán a trabajar esta es exactamente la filosofía de estos presupuestos actuar como si aquí no hubiese pasado nada una decisión imprudente donde las haya unos presupuestos continuistas si de vox dependiera la nota de estos presupuestos estaría clara suspenso rotundo he de confesarlo sus cuentas nos han dejado helados al igual que a la gente que está ahí fuera pasando frío sin poder trabajar

nefasta que ya no pueden tapar con la disculpa de que la pandemia es impredecible esa excusa se agotó hace ya unos meses señores del gobierno reflexionen no han convencido a nadie ni a la derecha ni a la izquierda sus cuentas

o mejor dicho se quedaron en aquel lejano dos mil diecinueve pero seamos realistas ustedes pueden hacer esto tienen el poder suficiente para ello pero el problema no es no habernos convencido a los grupos de la oposición la cuestión es la decepción comerciantes empresarios y personas vulnerables no están satisfechos los hosteleros me he pasado días visitando a muchos y me han contado de primera mano

de primera mano que no han recibido un euro o que lo que han recibido

tienen que ver sin embargo como se dilapidan ciento cincuenta millónes de euros en una televisión pública vasca que es la más cara de toda españa

ellos recibiendo limosnas cuando se les tendría que haber indemnizado por haberles obligado a cerrar sus persianas nuestros mayores nos presentaron este lunes un documento pidiendo entre otras muchas cosas que las mascarillas entren en la tarjeta sanitaria en cambio han preferido gastar en impulsar más aún el euskera

nuestros comerciantes se sienten estafados cuando ven la cantidad de recursos destinados a abrir embajadas en el exterior o lanzar una marca que nadie reconoce fuera de españa

millones de euros y recursos dilapidados y qué se encuentra uno al pasear por los centros de las ciudades vascas cierre abandono todo lleno de carteles de se vende y se alquila

más incluso que a potenciar deportes en personas con necesidades especiales o el deporte femenino o deportes con gran arraigo como rugbi o piragüismo sin embargo dan prioridad al frívolo sueño de una selección vasca de fútbol frente a las necesidades de otros deportes absolutamente infrafinanciados

derrumbados ante una situación que ha puesto patas arriba su vida

como si el covid no hubiera hecho estragos en nuestra sociedad han dejado clara cuál es su apuesta no renunciar ni por un segundo a su proyecto nacionalista

antes un país vasco arruinado que sin euskaldunizar esto es importante y la sociedad debe de saberlo nos obligan a apretarnos el cinturón a todos pero ustedes no renuncian a nada por el contrario tenemos la mayor cantidad de altos cargos políticos me preocupa la falta de prudencia ante la crisis que nos acecha una temeridad basada en el endeudamiento

millónes de euros para que siga la fiesta la fiesta de los políticos y que van a pagar las empresas y familias vascas

hay que decirlo alto y claro la deuda la pagaremos los de siempre la españa que madruga y las clases medias pero sin embargo qué hacen los partidos en el poder les recuerdo que algunos de los puntos de nuestra querida y desorbitada arquitectura institucional se podría recortar por ejemplo parlamento diputaciones ayuntamientos cuadrillas

que tienen problemas muy graves en el horizonte no solo la pandemia sino un envejecimiento que hará que dentro de treinta años sean muchos más los jubilados que los trabajadores no es tiempo de hacer reformas no es tiempo ya de valentía no es tiempo de admitir que no podemos duplicar las instituciones sin necesidad

abunde en duplicidades cuesta mucho más y es menos eficiente por supuesto a estas preguntas no puede responder la clase política vasca pues forma parte del mismo problema los movimientos globalistas buscan destruir el estado nación nos quieren separados pues así somos más débiles

les invitamos a que trabajen con valentía y generosidad y hagamos las reformas necesarias para que

nuestros hijos puedan ser los dueños de su destino y para eso tenemos que racionalizar recursos y buscar el objetivo principal de toda sociedad remar todos juntos desde vox creemos que otros presupuestos son posibles donde por cultura se entienda potenciar a todos por igual y no solo a una determinada visión del mundo frente a otra

hacia el objetivo de ser una referencia en investigación de delitos de toda naturaleza donde por educación

y no de adoctrinarlos en los preceptos de su ideología donde la prioridad sea ayudar a nuestros mayores y a las personas vulnerables y no imponer el euskera en vox entendemos que otros presupuestos son posibles los presupuestos en base cero donde cada nivel de gasto esté debidamente justificado acorde a las necesidades del momento y que no se pueden justificar por los ejercicios anteriores

mientras nos enfrentamos a la crisis económica más devastadora del siglo con el objetivo de que parezca que aquí no pasa nada

viven una realidad paralela su mundo no es el del resto de los vascos y si no admiten esto entonces

hacen estas cuentas a sabiendas de que son un ejercicio de responsabilidad absoluto

luego dirán que nosotros somos populistas pero que les quede clara una cosa no hay nada más populista que prometer y no cumplir no hay nada peor que mentir muchas gracias

presidenta lehendakari consejeras consejeros buenos días señorías la valoración de los socialistas vascos es exclusivamente política porque de política y de biología va la enmienda a la totalidad que ha presentado vox

del gobierno vasco con vox para negociar los presupuestos concluyó con la divergencia absoluta de las posiciones y el antagonismo de una visión de las cuentas públicas de euskadi

celebramos en su enmienda a la totalidad señora martínez se utilizan términos como esperpento irresponsabilidad gestión innecesaria e irresponsable similitud con el gobierno de españa gasto superfluo departamentos ideológicos como el de igualdad y el de cultura y política lingüística administración sobredimensionada

utilización política de un servicio público primar intereses políticos fracaso del estado autonómico oscurantismo desinformación

política partidaria y sectaria desestabilización institucional de la democracia cesión al globalismo riesgos a nuestra seguridad económica y social sectarismo modelo de renta de garantía de ingresos fracasado herramienta de corrupción legal brazo armado del nacionalismo vasco corrupción

recogido si hubiera transparencia este gobierno no dudaría un minuto

irresponsable desarrollo de agencia de colocación para fines programa de proselitismo estos son términos que recogen su enmienda a la totalidad

la renta de garantía de ingresos ha sido la mejor inversión para que la sociedad vasca sea una sociedad

no la cronificación de la vulnerabilidad sino la transición hacía una situación favorable de las personas vulnerables sus palabras y su enmienda pretenden derogar la política vasca los socialistas vascos nos presentamos a las elecciones del pasado mes de julio con una hoja de ruta

y es la que hemos además traspuesto en el acuerdo de gobierno garantizar la salud de la ciudadanía reactivar la economía y no dejar a nadie atrás y su aportación señora martínez es impugnar la política es practicar el antisistema ustedes juegan a poner en cuestión los pilares del estado democrático de la propia constitución porque no comparten

señora martínez hacer otros presupuestos y devolver el dinero a los ciudadanos como usted plantea no es la solución para la ciudadanía que tiene derecho

que tiene derecho a una educación pública y de calidad

a unos servicios sociales cuando se encuentra en situación de vulnerabilidad el populismo no es la receta que resuelve los problemas que tiene la ciudadanía vasca hoy y vox no quiere combatir la crisis lo que quiere es aprovecharse de ella a través del populismo

y las enmiendas parciales que han presentado seguimos sin conocer la política económica y social la alternativa en definitiva de vox

solo su defensa de un país uniforme donde no exista pluralidad donde no exista diversidad cultural donde no exista riqueza lingüística

porque para ustedes la única forma válida de pensar y de vivir es la suya y todos aquellos que no encajamos con su forma de vivir o de pensar sobramos sobramos en la españa democrática sobramos en euskadi y hasta euskadi sobra para ustedes los socialistas vascos estamos

ni su diagnóstico ni sus recetas ni su sensibilidad ni para con españa ni para con euskadi

celebrando el antagonismo de su visión de las cuentas públicas de euskadi para dos mil veintiuno que ha presentado el gobierno vasco muchas gracias eskerrik asko

nos habla de que no hay oscurantismo solo tenemos que mirar a la actualidad sanitaria para poderlo ver

en más detalle con lo que usted ha dicho lo que sigo diciendo es que desde vox décimos no a estos presupuestos unos presupuestos repito que abundan en el desgaste social en destinar los fondos a una arquitectura institucional que nos desborda por completo

es más en muchas ocasiones las impiden les pongo un ejemplo cuando uno se gasta todo su salario en pagar la hipoteca o el alquiler lo que va a pasar es que el dinero no llegará para comida luz y otra serie de servicios fundamentales

eso un bonito escaparate para presidentes autonómicos con instituciones y competencias a su servicio pero que no redundan en el beneficio de la sociedad

y con la crisis de la covid ha quedado claro no es una cuestión menor nuestras empresas cierran y las que no cierran son compradas a precio de saldo por capital extranjero perdiendo nosotros cualquier capacidad de decisión al respecto

ya lo hemos dicho en otras ocasiones que lo vemos necesario

el escándalo es endeudarse y gastar el dinero en cuestiones accesorias y no en proteger a nuestras empresas y familias

la de coger nuestros problemas estructurales y ponerles coto desde el reto demográfico pasando por la sobredimensionada administración y qué nos hemos encontrado unos fondos europeos next generation que sabe dios cómo los van a gastar no se especifica aun nada concreto

simple y llanamente imposibles de cumplir decían hace unos meses fin de la austeridad les exigiré valor dentro de un año cuando el mensaje sea toca apretarse el cinturón un cinturón al que ya

gracias presidenta señora martínez usted y su grupo
está en contra del estado de la autonomías y quiere volver a la estructura

sin reconocer el avance del estado y de la sociedad española y en concreto de la sociedad vasca y no es casual que vox intente impugnar el estado de las autonomías cuando es el que provee de los servicios públicos de los servicios sanitarios de los servicios educativos de los servicios sociales

y la intervención pública tiene que reducirse a la mínima expresión por eso ni hemos encontrado ni encontraremos en la enmienda a la totalidad ni en sus enmiendas parciales

en beneficio del interés general de la ciudadanía vasca los socialistas nos sentimos orgullosos de haber defendido las libertades de haber combatido el fascismo de haber sido capaces de ir adaptándonos a lo largo de nuestros siglos de historia para intentar a los retos que ha tenido y tiene la sociedad vasca usted en su discurso y en la defensa de su enmienda a la totalidad ha pretendido visibilizar unos presupuestos ajenos al desarrollo de una sociedad vasca moderna y preparada para afrontar los grandes retos y transformaciones que están promoviéndose en europa y a las que desde euskadi y en las que estamos dispuestos a trabajar como retos de hoy para tener un futuro cierto en cambio ustedes no solo no comparten sino que combaten

la igualdad de oportunidades el derecho de cada uno a pensar como quiera la libertad para poder expresarlo o la libertad para poder desarrollar sus ideas

porque estos son los presupuestos que plantean soluciones a las urgencias de la ciudadanía vasca y plantea soluciones a las necesidades y retos de futuro de nuestra sociedad porque son unos presupuestos progresistas porque son unos presupuestos que promueven la igualdad plena de las mujeres porque son unos presupuestos que parten del acuerdo entre partidos diferentes y son el reflejo de la pluralidad

y porque representan exactamente lo contrario al sectarismo a la desigualdad y al populismo nada más gracias eskerrik asko corcuera

jaun andreok egun on guztioi señorías defiendo hoy la enmienda de la totalidad que mi grupo el partido popular y ciudadanos presenta a

la devolución al gobierno de este primer presupuesto de la legislatura para su reelaboración no creemos que este sea el mejor presupuesto para los vascos en el año dos mil veintiuno ni para tampoco los departamentos concernientes

y hablando de departamentos tomo la palabra cuando todavía para asombro de los ciudadanos que nos escuchan la señora consejera de salud permanece en su cargo sin dimitir

hace días que cualquiera de esas dos decisiones y ninguna otra están plenamente justificadas usted mismo lehendakari

yo le creo le creo y debe ponerlo en práctica debe ponerlo en práctica

la situación para la consejera de sanidad es insostenible porque está bajo sospecha la consejera y estamos hablando lehendakari como usted sabe de la consejería de sanidad o la consejera de sanidad

el daño que hace a esa consejería es terrible cuando están muriendo decenas de vascos por la covid diecinueve todas las semanas y ven atónitos que dirigentes del pnv

en un fuego cruzado entre miembros del pnv no lo olviden un fuego cruzado entre miembros de su partido político si no dimite usted debe cesarla

que presentaron ustedes el presupuesto ante la cámara después del veinte de diciembre comparecieron con un trasfondo de dimisiones en aquel momento en salud que produjo ya una grave crisis y lo hicieron sin saber a falta de horas cómo sería la navidad ni cuándo llegaría la vacuna ni que sería de los fondos europeos cinco semanas después del sálvese quien pueda en salud hemos asistido también el desmoronamiento del departamento

descontrol relatado hace pocas horas por la que recordamos es todavía consejera de salud en esta misma cámara en este tiempo

a verse desacreditada como institución por la actuación de los responsables sanitarios y aquí estamos

pero sabiendo que estamos mucho peor que en navidad en pleno repunte de pandemia con falsedades más dimisiones vacunaciones secretas

y en la total opacidad sobre el plan de vacunación que quizá no existe o existe para unos más que para otros para tener la imagen completa la radiografía

lío de cada día por la famosa cogobernanza o la codecisión en relación con los fondos europeos

como el del pnv que reclama relación directa con la unión europea para debatir la lista de proyectos y lamentan claro debatirlos a través de españa como si los vascos pudiéramos recibir algo de europa sin formar

entre aquellas comparecencias y este debate recibimos el baño de realidad económica y social del cierre del dos mil veinte un baño de realidad que no queremos ni podemos dejar de lado decenas de miles enfermos tres mil fallecidos por la pandemia

casi veintiuno mil quinientos afiliados vascos menos a la seguridad social

con un treinta por ciento de contratos menos firmados lo peor lo saben para la hostelería siete mil ochocientos afiliados menos más de un tercio del total seis de cada diez solicitantes de ayudas

y para los jóvenes nuestros jóvenes con un incremento del treinta y seis por ciento en el número de parados por decirlo fácil

creado en el dos mil dieciocho y dos mil diecinueve con regreso a las cifras del año diecisiete esta realidad es nuestra referencia en este debate porque un presupuesto

por eso salvar vidas y empleos es nuestra prioridad y además nuestro programa lo dice así y debería serlo de cualquier administración responsable necesitamos un presupuesto para hacer frente a la pandemia y sus efectos sociales y económicos y esto como decía al comienzo no lo es

hoy señor azpiazu aquí el gobierno del señor urkullu pues nos han presentado un presupuesto

desde la primera línea del texto articulado señor azpiazu porque para empezar el presupuesto

la totalidad de los ingresos y gastos del gobierno vasco en dos mil veintiuno incluye previsiones ya superadas por la realidad como la recaudación de las diputaciones forales que alimenta vía aportaciones este presupuesto les recuerdo

revisaron ustedes las previsiones del crecimiento de la economía vasca para dos mil veintiuno

ese recorte supone también una bajada en la recaudación foral los ingresos serán menores que los que hoy debatimos y ustedes con su mayoría van a aprobar en cambio otros ingresos los de los fondos europeos no existen en sus cuentas

en los dos próximos años fondo destinado a educación sanidad y servicios sociales que percibiremos en parte en dos mil veintiuno y que ni mencionan otro tanto sucede con los fondos next generation de los que según los días esperamos recibir

mucho listado de proyectos seleccionados de forma más o menos opaco pero ni un céntimo en el presupuesto ni un céntimo

de incluir artículos y páginas enteras de disposiciones que dejan manos libres al gobierno para la futura incorporación

de fondos europeos de hecho una autorización para hacer literalmente lo que quieran o les convenga para no aplicar la ley de régimen presupuestario para la resignación de fondos y límites entre gasto corriente e inversión apruebe esta cámara lo que apruebe

ningún control parlamentario por lo tanto sobre los fondos europeos y también

se financien con cargo a esos fondos europeos por eso décimos que es un presupuesto falso porque no contempla todos los gastos y todos los ingresos que debería

y falseado pues desde el primer día pueden burlar lo que esta cámara apruebe sin límites efectivos nuestras enmiendas por lo tanto plantean límites a la transferencia de fondos

y exigimos en relación con los fondos europeos su inclusión en los presupuestos control parlamentario efectivo de su gestión pleno respeto a la ley de régimen presupuestario y rendición de cuentas del gobierno vasco ante la cámara nada de esto existe hoy en este proyecto de ley

para mirar hacia otro lado mientras ustedes hacen del dinero público capa y sayo

además sus cuentas nos llegan extraordinariamente podemos decir condicionadas condicionadas sobre todo por sus pactos con el gobierno sánchez iglesias

incertidumbres improvisaciones cuando no servidumbres ante los portazos de illa o de sánchez

más o menos escarmentados de anteriores pactos y con diferentes responsabilidades en cada ejecutivo y en cada cámara pero las mismas fuerzas políticas la misma baraja de cuatro palos pnv psoe bildu podemos se reparten entre ustedes más allá de esto cualquier posibilidad de acuerdo o negociación está vetada lo sabemos sabemos que nuestra enmienda representa la única alternativa real

esa gestión que tanto pesa sobre este presupuesto al agravar cada día la crisis económica y social que también deja sentir sus efectos sobre el tejido económico y social de nuestra tierra puede que sus pactos favorezcan algún interés del pnv pero tenemos muy claro que el interés general de los vascos y del conjunto de los españoles no pasa por apoyar

esta negociación tan limitada y predeterminada en efecto incorpora en euskadi los rasgos más preocupantes de la gestión de aquel gobierno esos condicionamientos

el primero por ejemplo no habrá reforma fiscal ni reducción de impuestos así lo ha el señor azpiazu

no importa que lo pactaran con el pp en los presupuestos para el año dos mil diecinueve con el compromiso acuérdese de aplicarlo en el año dos mil veinte

lo incumplieron como incumplieron todo con podemos el año pasado si no se lo digan ellos no importa que españa sea caso único en europa subiendo impuestos en plena pandemia

la senda trazada por su socio el señor sánchez nosotros seguimos defendiendo que hoy todavía más que en el dos mil diecinueve es imprescindible una reforma fiscal una reforma fiscal que como en toda europa deje mayores recursos en manos de las familias vascas una reforma que impulse la reactivación económica y ayude también a salvar empleos una reforma por cierto de la que serían beneficiarios más golpeados por la crisis y me estoy refiriendo a los hosteleros a los comerciantes a los autónomos a las pymes que verían incrementada su renta disponible así lo seguiremos defendiendo y ustedes lo saben

incapacita al partido nacionalista vasco para pactar una reforma fiscal seria y eficaz o quizá simplemente

otro efecto concreto de sus pactos otro ejemplo es el acoso a los centros concertados dijeron que la ley celaá no tendría ningún impacto en euskadi falso el pnv no solo ha votado la ley años racaneando con los centros concertados da igual que hablemos de primaria secundaria bachillerato educación especial o fp y ahora aprobada esa sectaria ley celaá

el importe del módulo de funcionamiento y mantenimiento por aula ese módulo que lleva más de una década congelado tampoco lo van a subir en el año dos mil veintiuno

con nuestras enmiendas les exigimos que cumplan su palabra que garanticen que no habrá impacto de la ley celaá sobre el alumnado sobre los centros concertados y sobre las familias vascas

como usted sabe lehendakari casi uno de cada dos alumnos vascos no solo se trata de aprobar muchos programas que por supuesto hay que hacerlo programas

es la salud también de nuestros hijos pero además hay que recuperar esos diez años largos de congelación del módulo de funcionamiento y mantenimiento y yo creo

de que los importes de dos mil ocho o dos mil diez no permiten a los centros cubrir

y cuando se refuerzan las dotaciones para una de las redes sostenidas con fondos públicos la red pública y se recortan para la otra la concertada lo que hacen es discriminar

de la ciudadanía vasca por eso hemos planteado un incremento del cinco por ciento en esos módulos para el año dos mil veintiuno parece claro por tanto

y de sus pactos todo lo malo se pega siempre en perjuicio de los vascos y con el voto del partido nacionalista vasco horrexegatik aurrekontua faltsua da

dicho todo eso qué han hecho ustedes y qué haríamos nosotros desde la coalición

primero el presupuesto privilegia al gobierno

pero ustedes han comenzado por subirse el suelo han aumentado altos cargos asesores y demás nombramientos digitales casi hasta trescientos personas y a los tres meses en un año con inflación negativa se suben un cero coma nueve por ciento el sueldo no sabemos si es un bonus por la buena gestión o un incentivo para mejorar

la alternativa es clara limitación proponemos a doscientos altos cargos y asesores sin incremento de retribución en dos mil veintiuno ni para ellos ni para los miembros del gobierno y prohibición de las indemnizaciones pactadas para el personal directivo de entes y sociedades públicas así como prohibición

exigiendo que existió lo recuerdan y que ustedes inexplicablemente ahora rechazan volver a implantar

elemental esperamos que nos acepten las enmiendas

segundo su presupuesto eleva la presión fiscal es decir

sectores que están tardando en recibir las ayudas prometidas siempre lejos de los importes necesarios los autónomos han visto incrementadas sus cuotas a la seguridad social

con el apoyo del partido nacionalista vasco y también el gobierno vasco

la presión fiscal eleva el importe de numerosas tasas y mantiene el canon del agua en términos de más de dudosa legalidad fomentando despilfarro y el incremento de precios a las castigadas familias vascas nuestra respuesta a tanto disparate la conoce impulso de una verdadera reforma fiscal un acuerdo con fuerzas políticas y diputaciones forales como ya he explicado antes ninguna tasa en la ley de presupuestos y eliminación del canon del agua también conllevaría y además apoyo por tanto a los sectores más golpeados por la crisis que serían los primeros beneficiarios

además nuestras enmiendas concretan el apoyo a esos sectores sobre los que se está cebando la crisis como les decía anteriormente especialmente hostelería autónomos

cultura necesitamos un verdadero plan de rescate para la hostelería hemos incluido setenta millónes más a fin de alcanzar los doscientos millónes que hemos propuesto durante estos meses otros sesenta y cinco millónes deberían destinarse a ayudas directas

y otros catorce millónes a los comerciantes que están pasando las peores rebajas después del peor año en muchas décadas y también hay que tener en cuenta a las familias vascas con crecientes problemas para la conciliación de la vida laboral y el cuidado de sus hijos

millónes esperemos que sean ustedes capaces de desarrollar los programas y hacer llegar el dinero a las familias porque en dos mil veinte fíjese

han quedado cerrados en el cajón y no habrá sido por falta de necesidad tercero

a esos funcionarios a los que han querido cargar con la responsabilidad del bochornoso retraso en el plan de vacunación y sin duda alguna

y mantiene la suspensión de sus derechos en relación con la jubilación forzosa o la posibilidad de prorrogar el servicio activo de la edad de jubilación nosotros hemos propuesto sencillamente la supresión de esas disposiciones en el texto articulado que en nuestra opinión vulneran esos derechos

hipertrofiado sector público antes he criticado la continuidad en el gasto corriente pero hay que ir más allá necesitamos con urgencia adelgazar racionalizar un sector público que lastra nuestros presupuestos y que no se fundamenta en principios de eficiencia y eficacia

cuando uno se adentra en el denso bosque de sociedades entes o fundaciones que dependen de este presupuesto y todavía es peor la impresión ante partidas dependencias o programas de exclusivo interés partidista unos son muy deficientes en su cometido otros

en algunos casos no está muy claro lo que hacen o compiten deslealmente con el sector privado si estudiamos los presupuestos encontramos que muchos se justifican

y otros en fin obedecen a una estricta óptica nacionalista

hablamos de embajadas y de otras cosas aquí hay que abrir el debate sobre estos temas y hay que replantear el futuro de tanta estructura o programa que son manifiestamente mejorables

nuevas representaciones del gobierno vasco en el exterior en dos mil veintiuno con la que está cayendo

años en las que ya existen de verdad vamos a seguir mandando dinero a ikastolas en francia como si fuéramos una ong ayudando a un país en apuros de esa ong no será preferible mejorar de inglés de nuestros alumnos y dotar de más dinero en esos apartados de verdad no hay nada que hacer mejor o mandar dinero en lanbide señora mendia que lamento que no esté hablo de lanbide sí

por su dirección estructuras y medio no por sus trabajadores ojo el mismo lanbide para cuya reforma hemos gastado medio millón de euros y que ahora

se puede tirar así el dinero público de verdad creen que basta con maquillar un poco lo que ya tenemos

cientos de millónes pagados indebidamente es decir pagados a quienes no tenían derecho

no se me olvida tampoco su nefasto balance durante la pandemia y frustración de sus usuarios

cuando ya había prescrito el plazo por cosas no muy diferentes acaba de caer el gobierno

y de verdad en otro tema creen también que no hay que hacer nada en euskal irrati telebista

la pérdida de ciento cincuenta millónes al año que serían como tres senados por ejemplo en la situación presente es decir estamos hablando de cuatrocientos mil euros diarios de dinero público que se van por ese sumidero repito

y cada uno de los días del año etb en concreto es una televisión que pagamos todos los vascos

de todavía menos es probablemente el medio público

sectario de toda españa pero si somos dos millónes de vascos cada uno de nosotros aporta setenta y cinco euros al año en impuestos para mantener euskal irrati telebista

es mucho dinero para mantener una televisión que es una ruina la reforma que ustedes no están dispuestos a abordar es ya inaplazable una televisión al servicio de todos los vascos con un coste razonable y una calidad que justifique su existencia hoy no tenemos nada de eso solo un agujero

voraz de recursos públicos y así podríamos seguir desgranando

todo un rosario de dislates económicos y de dislates de gestión

de rectificar nosotros sí nosotros hemos hecho un esfuerzo de identificación del gasto corriente prescindible

en nuestra administración hemos puesto el acento en algunas partidas programas de gasto entes o sociedades

cuya reforma constituye diría yo una demanda y una necesidad social no se puede tomar más el pelo a los ciudadanos por eso a través de más de ochocientos enmiendas

reasignado más de cuatrocientos millónes de gastos dirigiéndolos a nuestro objetivo fundamental que es salvar vidas y es empleo qué proponemos hacer

dirigirlos como decía a ese objetivo salvar vidas y empleos eso significa atajar la situación presente definir y ejecutar de una vez la campaña de vacunación

envejecida como es la nuestra porque harán falta varios años la legislatura entera desgraciadamente para recuperarnos y recuperar la senda del empleo para las nuevas generaciones

deuda que nos viene encima por eso es importante gastar bien y evitar despilfarros dónde creemos que hay que poner el acento pues en primer lugar

la sanidad para empezar haría falta lo que no tenemos una consejera con credibilidad y capacidad para gestionar un departamento tan fundamental pero además

para la que hemos propuesto incrementos de más de cien millónes de euros

los centros de atención primaria y los pac cerrados de deusto y san martín deberían ser los principales destinatarios a ello

y la situación de la atención primaria ante la tercera ola de la pandemia lo han puesto una vez más de manifiesto también en dos mil veintiuno deberíamos ser capaces de ejecutar

en centros de salud y hospitalarios por importe de otros veinte millónes de reforzar la red de transporte sanitario en los tres territorios cinco coma seis millónes y de poner a disposición de salud todos los recursos precisos en las partidas covid por eso las hemos incrementado en veintiuno millónes que están mucho mejor en manos del departamento que en ese cajón de varios que llamamos gastos de diversos departamentos como usted sabe y no es aplazable la creación de un programa de enfermero escolar

cada centro debería contar con un apoyo de este tipo que refuerce la prevención y la capacidad de reacción ante posibles brotes de la pandemia en los centros lo que proponemos es la puesta en marcha de un programa piloto para el curso dos mil veintiuno dos mil veintidós dotado con tres coma siete millónes de euros por último nos parece una cuestión de sensibilidad reforzar también la salud mental

desgraciadamente ha afectado a muchos de nuestros conciudadanos ayuda un año después son momentos complicados y muchos vascos como tantas otras personas en todo el mundo van a necesitar la ayuda de profesionales especializados

es un gasto socio sanitario manifiestamente necesario por cierto aunque no sea un departamento del tema de salud sí hablamos de salvar vidas está a punto de cumplirse un año del derrumbe del vertedero de zaldibar

de joaquín beltrán no queremos que la tragedia se repita y por eso hemos planteado la necesidad de una auditoría externa de todos los vertederos similares existentes en euskadi creo que son docena y media queremos tener la seguridad de que su situación no tiene nada que ver con la que motivó la catástrofe

reforzar el presupuesto para salvar empleos para salvarlos hoy y afrontar mejor la recuperación durante los próximos años eso significa más dinero en educación empleo e inversión productiva ya me he referido antes a la educación al hablar de la enseñanza concertada pero apoyar a las familias y preparar el futuro requiere más

avanzar en la gratuidad de haurreskolak la gratuidad del ciclo cero tres tiene implicaciones educativas y también en la conciliación de la vida familiar por eso hemos planteado que más de seis millónes de euros se destinen a esa finalidad

inserción laboral de nuestros jóvenes y para su competitividad queremos reforzar ese objetivo con diez millónes de euros y además hemos planteado la creación de programas de innovación educativa

que amplíen y diversifiquen la formación que aporta nuestra escuela y amplíen la futura

para poner en marcha estos programas es ahora cuando

especialmente a los más jóvenes ya ha hablado también de las medidas de apoyo a los sectores más golpeados por la pandemia

que la tarea es más compleja que tramitar ayudas coyunturales por importantes que sean

a gestionar en su mayor parte por lanbide está fuera de discusión que lanbide no es capaz de afrontar este reto por lo que en efecto debemos comenzar por su reforma y profunda transformación en todo caso es el momento

potenciar proyectos innovadores que precisan apoyo para su desarrollo impulsar iniciativas para mejorar la empleabilidad

y de crear programas para facilitar el retorno al mercado laboral de mayores de cuarenta y cinco años y de mujeres se trata de sectores que con la pandemia han visto evaporarse sus empleos y la posibilidad de recuperarlos a medio plazo como sabe por último el presupuesto debe de dar un decidido apoyo a la inversión productiva no a la creación de chiringuitos públicos para colocar a los amigos a dedo

o de servicios que buscan la transformación que la digitalización representa para tantos sectores de actividad

innovación en proyectos industriales porque pensamos en el peso del sector de la automoción o especialmente en el sector aeronáutico que consideramos estratégicos por el incluso de nuevas patentes e iniciativas de inteligencia artificial

no podemos dejar atrás a los pequeños municipios la digitalización clave para la educación no presencial o el teletrabajo también deben llegar

que todos pudimos detectar durante la pandemia remediarlo requiere un apoyo público probablemente con programas conjuntos de ayuntamientos

y hemos querido dar un apoyo específico a la economía social con cuatro millónes de euros aprobada la nueva ley no pueden quedar en el olvido a efectos presupuestarios desarrollar las previsiones de la ley no requiere solo elementos sino apoyo económico

incorporan ciento cincuenta millónes en los capítulos seis y siete

hospitalarios o del apoyo a inversiones de sectores maltratados por la pandemia también quiero destacar porque es un proyecto importante tres millónes destinados al proyecto de regeneración urbanística vía irún un proyecto de enorme impacto para esa ciudad

es mejorar los niveles de ejecución de estas partidas usted lo sabe en dos mil veinte apenas han llegado al cincuenta por ciento

es que no es una cifra muy diferente a la de los últimos años así ha sucedido con la encomienda de gestión de la y griega vasca rondando el cincuenta por ciento de lo presupuestado es decir

cuando financiamos con cargo a descuento del cupo y si hablamos de la variante sur ferroviaria es peor menos de un veinte por ciento es como si los compromisos de inversión del gobierno vasco fueran siempre aplazables si a esto le sumamos que cada mes de gobierno de pedro sánchez con el apoyo del pnv ha supuesto un mes de retraso en la y griega vasca el panorama ya es completo

ya ni siquiera sabemos para cuándo quedarán los accesos a las capitales en sus nuevos pactos con sus nuevos socios y hablamos de la inversión no lo olviden más importante de nuestra historia bukatzen ari naiz

hasta aquí las razones por las que hemos enmendado a la totalidad

nuestros argumentos son mimbres para la reelaboración que solicitamos si la devolución fuera aprobada sus cuentas como he dicho son manifiestamente mejorables

por eso pido el respaldo de la cámara para nuestra enmienda a fin de que tengan ustedes ocasión de reconsiderar y reelaborar sus cuentas

gracias presidenta señor iturgaiz los socialistas vascos compartimos la valoración negativa que realizó el gobierno tras la reunión con ustedes el pasado doce de enero cuando tras tres cuartos de hora de reunión esta concluyó sin opciones de seguir negociando

vasco populares ciudadanos a negociar y al desechar cualquier posibilidad de acercamiento una valoración muy negativa si le sumamos el hecho de que además de no aportar ninguna propuesta de mejora o modificación al presupuesto adelantaron en aquel momento la presentación de una enmienda a la totalidad

de que el ejecutivo ya tenía cerrado un pacto presupuestario con otro grupo partimos entonces de su negativa a negociar nada a no hablar

un pacto presupuestario con otro grupo un pacto además ya cerrado y han empezado ustedes la legislatura acertando de pleno porque dónde ven ustedes el acuerdo presupuestario con otro grupo parlamentario para estos presupuestos dos mil veintiuno

en la pasada legislatura tanto es así que las únicas novedades argumentales en esta enmienda respecto a la de los presupuestos dos mil veinte es el epígrafe es un presupuesto falso y que no hablan del fondo finkatuz las demás justificaciones son iguales

y en los contenidos en ambas enmiendas para tiempos que sí son diferentes así para su enmienda en los presupuestos de dos mil veinte planteaban como justificación

el acuerdo de bases partido nacionalista vasco euskal herria bildu ahora es el pacto sánchez iglesias

y en su actual enmienda además de indicar que el presupuesto es continuista y no hace frente a la pandemia señalan que incrementa y consolida

decían de los presupuestos dos mil veinte que estos penalizaban a los trabajadores del sector privado y de los presupuestos para dos mil veintiuno dicen que es un presupuesto que privilegia al gobierno

y ahora dicen que el presupuesto incrementa la presión fiscal sobre la ciudadanía y hablan cómo no del canon del agua señalaban en su enmienda a la totalidad para dos mil veinte que el presupuesto creaba nuevos derechos para altos cargos del gobierno y se seguía penalizando a los funcionarios ahora en esta enmienda a la totalidad se dice que este es un presupuesto

decían que no había simplificación del sector público vasco ahora vuelven a plantear que este es un presupuesto en el que sobra sector público y que además no se aborda

en los recortes en la educación concertada ahora dicen que los presupuestos para dos mil veintiuno

en plena pandemia y actualizan el párrafo diciendo que este es un presupuesto que está alineado con la ley celaá que eso debe ser muy malo porque

con la que estaban ustedes alineados en los presupuestos anteriores pues no ha sido nunca una ley ni contestada

en euskadi y en españa en fin hasta en la justificación de su alternativa presupuestaria el texto es casi igual o similar

entonces señalaban ustedes como alternativa el rigor en el gasto el incremento de la inversión el apoyo a pymes y emprendedores para crear un empleo estable y de calidad y unos presupuestos con servicios públicos bien gestionados en esta nueva enmienda a la totalidad para los presupuestos del dos mil veintiuno se considera como prioridad presupuestaria el esfuerzo y de nuevo el rigor en el gasto y si me he detenido en esta comparativa es para demostrarle la escasa altura de miras de su grupo ante la situación que estamos viviendo

y no participar con aportaciones para reforzar políticas necesarias en las actuales circunstancias sociales políticas y económicas que estamos viviendo

no hacen un diagnóstico realista de la situación sino que además siguen estelas partidistas que practican en otros territorios buscando excusas banales e inciertas para negarse primero a la negociación presupuestaria y poniendo después en la literatura de su enmienda una política absolutamente frentista pretendiendo la devolución de unos presupuestos

sino que son imprescindibles para salir de la crisis sanitaria y económica como una sociedad además reforzada y cohesionada social económica y territorialmente los socialistas vascos señor iturgaiz vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad de su grupo parlamentario por varios motivos

a su enmienda es un sí a unos presupuestos imprescindibles para cumplir los tres objetivos prioritarios del acuerdo de gobierno entre nacionalistas y socialistas vascos garantizar la salud de la ciudadanía la reactivación económica y recuperar el empleo en euskadi sin dejar a nadie atrás

permiten encarar este año dos mil veintiuno y el inicio de esta legislatura presupuestaria y políticamente

a la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia asentando además el presente pero mirando también al futuro con certidumbre y estabilidad presupuestaria son unos presupuestos expansivos sí

pero también unos presupuestos elaborados desde la responsabilidad y el rigor en la gestión presupuestaria y rechazaremos esta enmienda a la totalidad porque estos presupuestos

que avalan una hoja de ruta clara frente a la pandemia y la crisis sanitaria

la situación inédita que vivimos exige una respuesta sanitaria y de estímulos para la cooperación de la actividad económica estos presupuestos nos van a permitir afrontar y adecuarnos a la realidad en la que nos toca vivir así como afrontar los retos que como país teníamos antes de la pandemia y que esta

los presupuestos representan también la idea de concebir esta crisis también como un momento de oportunidad para abordar retos en la transformación energético ecológica

y la necesidad de reforzar la resiliencia de nuestro estado de bienestar

en estos presupuestos ha quedado perfectamente visible la apuesta por el valor de lo público tanto en su faceta emprendedora como en su faceta protectora y se visibiliza cómo hemos establecido una estrategia de gasto público para salir lo antes posible

y hacerlo además con pilares más robustos más competitivos y con mayor cohesión social por eso estos presupuestos manifiestan el compromiso del despliegue de las políticas públicas con mayor capacidad de apalancamiento y mayor efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía a corto y a medio plazo y hago especial referencia a este hecho porque parece que lo que les molesta señor iturgaiz y lo que destila

es una aversión a lo público y a la protección social se lo dije hace más de un año a su grupo parlamentario y lo vuelvo a reiterar por la coincidencia de ambas enmiendas hablan de los funcionarios como si no fueran los maestros y andereños que enseñan en nuestras escuelas el personal médico y de enfermería que nos atienden en ambulatorios y hospitales

uno coma ocho por ciento el doble de los sueldos públicos como si las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos sujetos sospechosos de querer vivir sin trabajar olvidando que la cuarta parte son pensionistas

son trabajadores pobres y que la mayoría del resto de personas perceptoras entran y salen de la red de protección en la medida en que se les ofrecen oportunidades cobrar la renta de garantía de ingresos no es ningún chollo no es ninguna lotería

de hace cinco años dependiendo de esta prestación hoy el mayor porcentaje de personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos señor iturgaiz son personas autóctonas y mayoritariamente mujeres que aspiran a no ver su situación cronificada aspiran a salir de esa prestación de la renta de garantía de ingresos derecho subjetivo y poder ganarse la vida dignamente trabajando y un par de apuntes más que son recurrentes para su grupo la educación concertada y la fiscalidad

la enseñanza concertada está cumpliendo un papel importante en un sistema que tiene como garantía la educación pública de calidad bien sea prestada directamente o a través de unos centros concertados que han conseguido a pulso

hace ya más de un año tras muchos meses de conflicto y de negociación colectiva

en la reforma laboral que ustedes hicieron y que se debe recuperar porque se centra en conseguir y consolidar derechos laborales y salariales y se han ganado

y el partido popular y ciudadanos en este caso su grupo parlamentario

elementos de distorsión cuestionando el presupuesto cuando no hay ninguna razón para ello porque ustedes también cuando hacían pactos presupuestarios apoyaban esta situación respecto a la fiscalidad reiteran una mentira sobre el compromiso de revisión del acuerdo firmado en dos mil diecisiete saben que esa revisión la íbamos a hacer tras una evaluación de los resultados en dos mil veinte aquí el

aquel acuerdo firmado unos meses después de la mano de elkarrekin podemos y euskal herria bildu rompe en álava la armonización fiscal a la que se habían comprometido

a la primera justificación de su enmienda a la totalidad que considera que este es un presupuesto falso porque el estado de gastos no incluye partida alguna relativa a los fondos europeos para luchar contra la covid diecinueve cuando ustedes mismos en esa enmienda hablan de probabilidad y de incertidumbre en el ejercicio y quiero dejar además constancia en el acta de la sesión de hoy lo que se dijo tanto en la comparecencia del consejero de economía y hacienda sobre las líneas estratégicas

para estos presupuestos dos mil veintiuno y que también con motivo del pleno monográfico que mantuvimos en noviembre sobre los fondos europeos y su carácter de adicionalidad a estos presupuestos cuando se señala la innegable repercusión en el documento presupuestario de la recepción de fondos europeos

este proyecto de ley se articula en un capítulo cinco con ocho artículos expresamente

es esta ley de presupuestos la encargada de terminar el puente de inserción de estos fondos en las cuentas vascas

pudiéndose crear además y así lo dice la ley por el departamento de economía y hacienda un programa multidepartamental que incorpore los nuevos proyectos vinculados al plan de recuperación

que contemplan un programa covid para salud de ciento ochenta y cinco millónes de euros para reforzar el personal en centros sanitarios ambulancias inversiones

pretenden además la devolución de unos presupuestos que tienen para educación noventa y cinco coma seis millónes en personal de refuerzo en conciertos educativos

un fondo covid de treinta y dos coma dos millónes de euros para sufragar las líneas de financiación de apoyo a empresas pymes y autónomos casi treinta millónes para conciliación familiar

quince coma dos millónes de euros para el comercio y turismo siete coma cuatro millónes de euros en lanbide de los cuales seis coma siete irán a complementar

hasta quinientos cuarenta y dos millónes del programa covid dos mil veintiuno que ustedes pretenden devolver ustedes no pretenden con su enmienda

perdón ustedes pretenden devolver con su enmienda quinientos treinta y cinco casi quinientos treinta y seis millónes de euros destinados

en los presupuestos de dos mil veintiuno en un año clave para la innovación y para la transformación digital

ustedes pretenden devolver unas cuentas en las que ocho de cada diez euros se destinan al gasto social ustedes pretenden devolver unos presupuestos de educación que suponen

del presupuesto de euskadi y ustedes pretenden devolver unas cuentas que destinan a salud

por persona estamos ante un ejercicio presupuestario determinante y excepcional no solo para las urgencias sino también para los retos de futuro a corto y a medio plazo

de toda la legislatura el reto es enorme los socialistas vascos nos hemos comprometido a superarlo reincorporan a las más de quince mil personas se han perdido su empleo

a través de un plan que con una duración de dos años incidirán aspectos

el emprendimiento y la adaptación de las personas desempleadas a las nuevas oportunidades en fin una serie de apartados de partidas

el doce de enero no tenían ninguna pretensión de negociar y menos de acordar y eso nos exige a los socialistas vascos en este caso rechazar la enmienda a la totalidad señor iturgaiz que ustedes han presentado que basándose además en datos que no son ciertos

además la oposición debe ser consciente de que nuestro proyecto de presupuestos tiene el aval de la mayoría social no es señor iturgaiz una cuestión de que sean o no presupuestos nacionalistas la ciudadanía ha apostado por nuestro programa nuestro proyecto y nuestro modelo

y asumiéndolo podremos construir más y mejor todas y todos remando en la misma dirección

está ya ha estado dispuesto a negociar para que partidos políticos con menor representación como es el suyo puedan plasmar sus propuestas en el proyecto presentado sin que ello implicase

el gobierno vasco se ha reunido con todos los partidos para negociar y ha negociado con aquellos partidos que no se han autoexcluido en la primera reunión como es el de su coalición señor iturgaiz en la primera reunión de negociación su grupo se autoexcluyó abriendo la conversación con frases como vamos a presentar una enmienda a la totalidad y porque además se sabe que tienen un acuerdo precocinado con el grupo elkarrekin podemos visto está como pitonisas no tienen ustedes precio es esta una posición negociadora de un grupo político

y otro ejemplo de su disposición son sus intervenciones señor iturgaiz diciendo que el grupo popular ciudadanos será el dique al nacionalismo ojalá el panorama cambie

en esta cámara tenemos experiencia en ello pero les animaría

a apartar la crítica estéril y constante y la confrontación política absurda porque estoy segura de que de haber querido ustedes este presupuesto contendría ámbitos en los que ustedes se podrían haber sentido representados no siendo ciertamente su propuesta hubiera sido positivo lanzar el mensaje de pactos más amplios la sociedad necesita soluciones

soy consciente de que todos los partidos de la cámara no lo vemos igual algunos tienden más al ombliguismo más aún cuando leo la enmienda a la totalidad del grupo

señor iturgaiz un objetivo cuanto menos curioso pero alejado de la realidad le voy a ofrecer datos ciertos

y sonantes presupuestos que incluyen un fuerte crecimiento en salud y educación con incrementos de doscientos treinta y seis y ciento sesenta y nueve millónes respectivamente flaco favor hacen ustedes a la sociedad vasca menospreciando el gasto corriente que efectivamente suponen estos servicios públicos salud y educación porque sí

y no es que se mantenga es que este presupuesto lo incrementa sin ninguna duda

en plena crisis sanitaria otro dato cierto el programa covid dotado quinientos cuarenta y dos millónes de euros distribuidos en distintos departamentos para que entre otras medidas

el programa financiero dirigido a las pymes y programa de estímulos a diversos sectores y sigo más inversión pública novecientos cincuenta y cinco millónes incrementando un seis coma cuatro por ciento

de nuevo sí lo repito para que quede claro casi ocho de cada diez euros se destinan a salud educación

señor iturgaiz reconociendo los conocimientos en el ámbito europeo de miembros de su coalición resulta incomprensible que argumente la falsedad de estos presupuestos porque no incorporan los fondos europeos unos fondos por cierto que ni siquiera europa ha aprobado aún en su parlamento

ni siquiera su gobernanza pero quiero tranquilizarle euskadi cuenta con un programa propio que usted conoce

los recursos que lleguen se integren en su presupuesto nuestro partido no es de hacer castillos de naipes somos más de construir sobre bases sólidas y trabajar con rigor certezas y honestidad

no pueden financiar actuaciones ya contempladas en el presupuesto ordinario ni gasto corriente criterio de adicionalidad y es lo que se ha hecho pero es que además salvo que ustedes me indiquen que pueden cuantificar el importe de los fondos mrr

no es posible consignar una cifra en estos momentos falso señor iturgaiz es calificar a estos presupuestos como falsos

de nuevo su faceta de pitonisas como se está comprobando las herramientas de predicción que emplea el gobierno vasco muestran que son eficaces

seis décimas de la cifra cierre que ha sido del nueve coma cinco por ciento

sí debiera poner en valor el esfuerzo y el trabajo de todos los profesionales que hay detrás de estas estimaciones más aún en una situación económica tan inestable indican adicionalmente que es un presupuesto condicionado por pactos con el gobierno sánchez iglesias

tienen aportaciones del partido socialista porque junto con el partido nacionalista vasco somos los partidos que apoyan a este gobierno los de iglesias ya creo que se han anticipado a los acontecimientos

no hemos conseguido llegar a un acuerdo aunque se haya intentado otro de los objetivos que ha empleado usted para referirse a estos presupuestos es que son continuistas

zazpiehun eta hirurogeita hamar gehiago gastu errealean las cifras hablan por sí solas

son unos presupuestos continuistas en el incremento de inversión y gasto público seguiremos en esa línea ustedes fueron parte de los presupuestos de euskadi del dos mil diecisiete y dos mil dieciocho y les agradeceríamos sus aportaciones y les agradecemos sus aportaciones por el bien común

redunda en el beneficio de la sociedad a su desarrollo económico y a la creación del empleo

se refieren ustedes también a la reforma fiscal y nos acusan de haber incumplido nuestros acuerdos con ustedes en esta materia quizá al no estar usted

pasada legislatura se le hayan escapado ciertos matices de los acuerdos yo los he repasado no se ha incumplido ni media coma porque en los acuerdos se habla de una revisión de la fiscalidad

salvo en estos debates rara vez les oigo críticas a este respecto por algo será

a usted y a su grupo citan en su enmienda a la totalidad la baja ejecución del presupuesto señor iturgaiz la ejecución presupuestaria global siempre en situaciones ordinarias ha rondado el noventa y siete noventa y ocho por ciento somos una de las comunidades autónomas que más ejecución de gasto realiza en el estado idéntica

en atención primaria no se ha ejecutado es por cuestiones administrativas como es el caso por ejemplo de la farmacia sociosanitaria de galdakao consecuencia de los recursos interpuestos tanto al pliego como a la adjudicación pero nosotros seguiremos con nuestro plan

en aras a mejorar la calidad de sus servicios bien se lo merece y así lo valora la ciudadanía la gestión de la crisis en el último sondeo disponible en plena pandemia

y en un seis coma cuatro las actuaciones del gobierno vasco en esta crisis sanitarias

saben que el modelo funciona y así lo valora la ciudadanía por tanto no intenten con cuestiones puntuales que hoy han vuelto a mencionar solapar el gran trabajo de miles de profesionales les agradecería que redireccionasen sus esfuerzos y que su objetivo

por todo ello clara y rotundamente le décimos que no a su enmienda a la totalidad porque como hemos podido comprobar está completo de falsos argumentos

califíquelos de nacionalistas y también de socialistas si me permite son unos presupuestos valientes para encarar con éxito los retos que venían del pasado y los nuevos que se nos presentarán retos como de la transformación energética ecológica la transformación digital y el emprendimiento capítulos todos con fuertes incrementos en sus partidas señal de que el gobierno apuesta firmemente por ellos y solo le cito unos ejemplos el cinco coma tres por ciento del presupuesto total

sumando ciento seis millónes del plan de digitalización plurianual al departamento de educación

el reto demográfico el modelo educativo y las familias que también usted cita la cuestión del modelo educativo

tenemos que mirar más allá y enfrentarnos a la realidad que es el reto demográfico el gobierno vasco adoptará una perspectiva integral yendo más allá de la natalidad o de la realidad rural

y gestionar el ciclo de relevo generacional tan amplio en la pirámide demográfica y para iniciar esta andadura este presupuesto prevé dos millónes de euros y otro dato respecto a las ayudas a familias que entiendo ustedes en su crítica se ciñen a las ayudas a las familias que se contemplan en el departamento de igualdad justicia y políticas sociales que suman según mi

nada más y nada menos que setenta y cinco millónes y en todo caso no sé si considerarán a determinas becas del departamento de educación partidas que suman casi noventa millónes

pero no deben obviar la existencia de otra serie de partidas con impacto directo en las familias que ustedes no consideran como entre otras la rgi y la prestación complementaria de vivienda que suman cuatrocientos sesenta millónes de euros las ayudas de vivienda al alquiler libre por un millón de euros la partida de cinco millónes de euros

y la consolidación y extensión de ayudas a la contratación para el cuidado de niños y niñas aumentado la partida hasta los cinco coma nueve millónes de euros para este gobierno

y en estos sectores tratamos de influir con el nuevo programa de apoyo financiero a pymes y autónomos que se está trabajando ya y se pondrá en marcha lo antes posible

de la ola de la pandemia ha estado acompañando y ayudando a las pymes y autónomos nuestro programa de gobierno más allá del capítulo autogobierno que ustedes también conocen

que incluirá un programa específico para pymes para reforzar los plan renove de maquinaria

programa de estímulos a diversos sectores por valor de quince millónes de euros y ciento cuarenta millónes para actuaciones extraordinarias y contemplarán nuevas actuaciones para los sectores más castigados

por tanto menos juicios de valor y más hechos y cifras contantes y sonantes beste barik bigarren txandan jarraituko dut

corcuera y berrojalbiz yo quiero agradecerles su tono ambas no la había localizado señora berrojalbiz agradecerles

discrepante lógicamente pero yo creo que siempre constructivo en un debate cada uno con nuestras diferencias lógicamente y que siempre como le decía para las posiciones de cada uno pues es bueno llegar a esta tribuna en esta democracia ver en qué cuestiones planteamos nuestras

una mención simplemente señora berrojalbiz cuando habla usted el dique al nacionalismo

ese dique al nacionalismo obligatorio obligatorio

que a veces incluso amenaza y dígaselo al señor sabas el gran titular lo dice su compañero de partido político

le amenazaban por lo tanto circunscrito al tema del nacionalismo obligatorio el famoso dique la señora berrojalbiz me comentaba en su intervención además de otros adjetivos que habíamos dicho

de esta enmienda a la totalidad que presenta el grupo partido popular ciudadanos

pero me recordaba también que el presupuesto era continuista le voy a explicar

continuista este presupuesto es continuista perfectamente reconocible respecto al aprobado con podemos en la pasada legislatura

por la pandemia debía exigir por lo menos nosotros lo pensamos así

importante en los planteamientos de las cuentas públicas pero ustedes lo que han hecho y lo que hacen un presupuesto precovid al que se le han incorporado programas partidas anticovid

y fíjese le voy a poner un ejemplo muy muy gráfico para toda la cámara fíjese si será continuista este presupuesto que el texto articulado no menciona la covid diecinueve ni una sola vez ni una sola vez

por lo tanto ni siquiera cuando hace referencia a los fondos europeos de los que usted

eso sí que es permítame que le diga un proyecto ajeno a la realidad el riesgo es que las cifras récord del presupuesto se conviertan en una oportunidad perdida porque

se utilizan para compensar los al menos ochocientos cincuenta y cuatro millónes de pérdida de recaudación y para pagar las partidas anticovid pero también para mantener e incrementar como si no pasara nada el gasto corriente y eso es lo que

no ha existido un replanteamiento de las cuentas públicas para eliminar tanto

a los sectores más golpeados por la crisis y tenemos que lograr que ese endeudamiento que pagarán desgraciadamente como le he dicho anteriormente las próximas generaciones

tengan por lo menos la máxima rentabilidad social y económica que es lo que

incapaces ustedes en el gobierno de reconocer y traducir a cifras una nueva realidad creada por la pandemia que va insisto desgraciadamente ya

solo hay que ver cómo está la cámara está condicionando toda la legislatura

a los sucesivos presupuestos sin duda alguna por lo tanto si ustedes no quieren acometer reformas imprescindibles yo creo que por eso nosotros tenemos que hablar

de oportunidades perdidas el señor azpiazu en su intervención y lo ha dicho también la señora corcuera me comentaba

que no se pudo llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno en conseguirlo ustedes dos señoras han citado

de otra manera que trasladaba

será con otros será con otros señora corcuera y señora berrojalbiz

sabemos sabemos cómo son los acercamientos del gobierno cómo son los tiempos del gobierno porque lo comprobamos y lo supimos en otras legislaturas

si es que nosotros apoyamos presupuestos de un gobierno de sus partidos políticos

lo recuerdan y sabíamos cómo venían ustedes y cómo se acercaban y cómo quedaba y cuáles eran los tiempos y cuáles eran las circunstancias de cada momento por eso ahora ustedes

que nos han pedido una adhesión una adhesión a un presupuesto cerrado y finiquitado eso es lo que nos han venido a hablar ahora

con los compañeros de ciudadanos pero lo conocemos bien sabemos cómo se hacían las cosas

ustedes cortejaron a otros grupos con la intensidad que hacían con el partido popular en otros tiempos

lo que ocurre es que otros les dieron calabazas por la razón que sea

ellos pero ustedes y ellos saben perfectamente lo que ocurría porque pitonisas cuando nos dicen a nosotros los del partido popular o a mí oiga dígaselo también a los medios de comunicación que nos trasladaban nos trasladaban a todos

y porqué y nosotros veíamos claramente cómo eran las circunstancias que ustedes utilizaban que hacían con esos partidos políticos lo que no hacían con la coalición partido popular ciudadanos

de frentistas por lo menos lo ha utilizado no sé si lo quería decir de frentista a la

partido popular ciudadanos señora corcuera y se lo digo a toda la cámara y lo saben los diputados

pueden recordar recordar lo que les voy a decir desde el debate de investidura desde ese debate nosotros ofrecimos nuestro apoyo y nuestra mano tendida

digo más y sigue esa oferta y esa mano tendida

para ayudar a salvar vidas a regenerar la economía a crear empleo

y nuestro compromiso desde el partido popular ciudadanos como decía sigue firme y sigue extendido a ustedes pero no debemos circunscribir a todo ello

en hechos y no en palabras y cuando estoy hablando de hechos en mi primera intervención y se lo vuelvo a decir pensemos en los ciudadanos vascos

los problemas de esta tierra tienen nombres y apellidos y se llaman

la tortura para los hosteleros de no saber si abrirán la persiana mañana

de si podrán seguir abriendo sus comercios o a los autónomos si pueden aguantar o si las pymes tendrán que frenar o para su actividad

en la vacunación sin preferencias a los que tienen carnet de un partido político estos son los problemas reales de esta tierra señoras

esos presupuestos como les decía anteriormente ni citan en el articulado la palabra

mire señora corcuera será que no es culpa nuestra de la coalición partido popular

yo creo que no es culpa nuestra que reincidamos porque los que están reincidiendo y los que vuelven a reincidir son ustedes

en los errores y que aplican reformas todos los años que luego no las cumplen son ustedes quienes presentan el presupuesto de siempre con un apéndice para hacer frente a la pandemia un presupuesto que nos lleva a un callejón

a un callejón sin salida porque yo le digo señora corcuera que no afrontar reformas es agravar el futuro no su futuro ni el futuro de su partido político o del gobierno vasco

de todos los vascos y en ese planteamiento están ustedes sobre el sector público va terminando el tiempo pero quería decirles

qué hay claro que se acuerda al que apoyamos gratis por cierto el partido popular también se acuerda claro

esas duplicidades costaban unos cuatrocientos millónes al año a las arcas públicas

de que eso hay que eliminarlo van a tener la oportunidad cuando el señor

hemos criticado la subida de sueldo al gobierno al gobierno no a la de los funcionarios y yo creo además que

de verdad reconducir al mismo importe la subida de la

sobre todo el tema de los fondos europeos

usted me imagino que se fía del señor sánchez y yo lo siento

ni del señor iglesias porque para aprobar los fondos europeos sin saber cómo vendrán cuánto vendrán en qué tiempo vendrán en qué plazo vendrán fíjese si el lehendakari ha tenido que ir a donde el señor lo hemos visto

esta misma semana donde el señor sánchez donde el presidente del gobierno para decirle oye qué hay de lo nuestro qué hay

porque se ha tenido que reunir para decirle qué hay de lo mío cuánto va a ser cuánto y cuándo

bildu aprueban que el señor sánchez

tener toda la capacidad para hacer lo que quiera sobre los fondos los fondos europeos tengan cuidado porque igual se llevan una sorpresa a la hora de

y para terminar nos hemos la baja ejecución de la inversión es verdad que es habitual

es habitual verlo así es histórico yo diría pero no es una virtud de su gobierno

socialista sino yo creo que es más un grave defecto que no parecen dispuestos

nosotros sin duda alguna creo que más que nunca es necesaria la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo del partido popular ciudadanos porque además de continuista además de falso además de condicionado son unos presupuestos que en estos momentos no necesita

más cercanos a atajar la crisis la pandemia de la covid diecinueve solucionar los verdaderos problemas reales que tienen los ciudadanos del país vasco eskerrik asko

presidenta mire señor iturgaiz una enmienda

una alternativa a la propuesta que hace el gobierno y la del partido popular y ciudadanos es una alternativa a la propia política que al menos el partido popular ha venido realizando hasta la pasada legislatura cuando pactó con el gobierno los presupuestos de euskadi mire ustedes por renunciar

han suscrito para apoyar la caravana solidaria con los refugiados del sáhara no sabemos si es por eso que tan feo le luce

de firmar cosas con euskal herria bildu que luego les recuerdan que ustedes llevan años haciéndolas y ahora

hasta aquello que defienden señor barrio verdad quién ha visto y quién lo ve yo siento el papelón y también renuncian a defender el incremento de la

al menos para los pensionistas como hacían hasta hace un año el tono insultante para los perceptores de este

más vulnerables de nuestra sociedad sembrando la sospecha de que son unos aprovechados no es nuevo señor iturgaiz no lo hemos oído de manera recurrente años anteriores esto lo hemos oído además demasiadas veces incluso

y por si no lo tienen claro el grupo socialista votando no a su enmienda a la totalidad va a apoyar sin fisuras un proyecto para garantizar la salud de todas las personas residan donde residan para reconstruir social y económicamente euskadi y para no dejar a nadie atrás ese fue nuestro compromiso electoral

y es lo que vamos a hacer no dejar a nadie atrás y si no les gusta la renta de garantía de ingresos sepan que vamos a hacer un sistema de protección social aún más sólido

y no lo hace y que lo haga además con más intensidad donde haya menores y donde haya pensionistas y sobre todo que consiga que cada vez

porque somos capaces de impulsar un empleo de calidad lanbide ya ha empezado a cambiar y los agentes se han comprometido a mejorar este proceso los agentes sociales sí quieren arrimar el hombro mientras que el pp y ciudadanos prefieren seguir en el rincón señalando con el dedo no se sabe qué todo su discurso destila un complejo grande

o que el organismo lleve un nombre en euskera como la propia lanbide al que su enmienda

embajadas es un enorme complejo que los socialistas además no entendemos porque todas estas cosas las han hablado ustedes en el pasado además un pasado no muy lejano

antes de la pandemia es verdad pero antes también de que el pp dejara de gobernar españa y esa herida es la que sigue supurando por la enmienda a la totalidad que han planteado

estos presupuestos apuntalan el proyecto que lidera pedro sánchez sin ninguna duda porque si bien es deseable que las políticas de los gobiernos estén alineadas en este caso

en este momento crítico de la historia de nuestro país es imprescindible dicha alineación no sé si todavía no se han enterado pero en efecto estamos en un momento

la fortaleza de nuestro sistema a los socialistas se nos medirá por una apuesta inequívoca por alinear lo que hacen nuestros ayuntamientos con nuestras diputaciones con el gobierno vasco con el gobierno de españa y con europa y no podemos estar más orgullosos de ello mire señor iturgaiz

aplíquese lo de consejos vendo pero para mí no tengo porque ni cuando gobiernan

presupuestos están hablando ustedes de las mismas cosas plantean falsas expectativas y lo que decía la señora berrojalbiz falsas expectativas las justas

con gaseosa se dice que hemos pedido una adhesión a un presupuesto cerrado

decían ustedes que había un acuerdo con otro grupo parlamentario y no es verdad a la vista está decían ustedes que los medios les comentaban

de verdad funcionamos en política con los medios a través de lo que dicen los medios no es más fácil cuando se sienta usted el día doce de enero decirle

al consejero de economía y hacienda qué hay de esto

de intentar pactar con los grupos porque le hubiesen dicho lo que le dijimos desde el minuto

usted tiene que ser consciente de eso menos mirar los medios y más estar en la reunión a lo que uno tiene que estar porque si no pasan estas cosas que uno mete la pata decía usted duplicidades en el dos mil nueve claro estaba allí pero es que era el dos mil nueve

y ha llovido y ha pasado el tiempo y ha habido leyes y ha habido reformas y la gestión y los servicios han cambiado y se han modificado y el gobierno ha cambiado y se ha ido modificando y se ha ido adaptando a las nuevas no hable usted de dos mil nueve

sigue vigente en todas sus facetas hoy dos mil veintiuno y por último me decía usted y le agradezco además el tono que sigue usted con la mano tendida pues mire

y no buenas razones porque aquí mucha mano tendida no ha habido y a los hechos me remito y bueno decía usted que

yo creo es porque era más fácil volver a repetir la enmienda

que tener altura de miras y ponerse a ver dónde se puede arrimar el hombro muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

un ecosistema atractivo en lo social ahí el destino del setenta y siete coma ocho por ciento del presupuesto a políticas sociales en infraestructuras

en factores económicos y fiscales en condiciones laborales en cultura es un todo señor iturgaiz y además hay que crear una estabilidad política otro atractivo

estabilidad política que afecta directamente al bienestar y a la atracción del talento la inversión la industria y ahora ustedes pueden sumarse a la ola de la estabilidad en euskadi

es el momento de crear consensos para una euskadi más fuerte más competitiva

al que si la oposición se quiere unir crearemos un ecosistema atractivo para euskadi si me centro en uno de los factores el atractivo económico para crear el citado ecosistema atractivo

usted señor iturgaiz también ha citado me gustaría remarcar nuestro gran trabajo histórico

un sistema solidario de riesgo unilateral que exige mucha responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y gracias a ello también hemos conseguido este nuestro ecosistema atractivo

por cierto aquí su grupo habla de política industrial pero quién habla de ello en madrid el partido nacionalista vasco tenemos el plan de ciencia e innovación

una apuesta por la internacionalización veintitrés millónes de euros para ello

hasta la última milla esto es que llegue a las pymes y para ello

emaitek plus sesenta y ocho millónes de euros elkartek cuarenta millónes de euros bikaintek cinco coma seis

cincuenta y nueve en salud y así hasta los quinientos treinta y cinco coma ocho millónes de euros o los datos en los que se observa un aumento de empleo en servicios intensivos en conocimiento del treinta y seis por ciento en dos mil trece al treinta y ocho coma cuatro en bi mila hemeretzi y el mantenimiento del empleo en manufacturas de tecnología alta media alta en un ocho coma siete desde el dos mil trece a bi mila hemeretzi o los incentivos fiscales

un instrumento de participación en grandes empresas con vocación de largo plazo para contribuir a su arraigo en la economía vasca

gracias a nuestra autonomía a nuestros derechos históricos por los que tanto hemos trabajado aunque otros partidos políticos que forman su coalición sus socios hayan hecho un discurso muy alejado de este enfoque

presentada a consecuencia del acuerdo entre el gobierno de españa y esquerra republicana sobre la recentralización defendiendo en su iniciativa lo siguiente defendiendo nuestra autonomía fiscal y es lo que dicen y financiera y la legitimidad de nuestras figuras tributarias adaptadas desde el respeto al concierto económico visto su papel

y nuestro autogobierno ya que solo veo mensajes contradictorios en diferentes instituciones como las de su grupo en madrid

otro factor que le voy a recordar en esta línea de la recentralización aunque el gobierno de españa mantenga claras asimetrías entre territorios aunque madrid sea un sumidero recursos tractor radial la conexión mediterránea la capital del reino

nosotros seguiremos manteniendo nuestra potencia económica ante todo ello seguiremos defendiendo aquí en europa y donde sea

más primero apoyando el emprendimiento innovador no les he oído citar que europa ha

por su labor de apoyo a la transformación digital de las pymes vascas

una política clara priorizando en estos delicados momentos la salud destinando del treinta y tres por ciento del presupuesto y a la educación destinando el veinticinco por ciento del presupuesto

pero no critican el presupuesto de fondo pero sí le voy a matizar que sí que este presupuesto incluye un por menor de gastos que incluye un programa covid entero la memoria incluye justificaciones de la pandemia

y es ridículo decir que porque no se pone el nombre del virus en el texto articulado estamos en presencia de unos presupuestos continuistas argumentos que se caen por su propio peso porque el pnv tenemos claro qué país queremos

a ustedes no les gustan e i te be ni el euskera ni las delegaciones internacionales del gobierno vasco que tanto valor aportan a nuestro tejido económico y social

y ya no es que algunas de sus enmiendas sean factibles o no pero la reducción y replanteamiento del euskera y de ciertas entidades va en contra de nuestra

y se lo explicó las delegaciones del gobierno vasco

pero le he decir señor iturgaiz que nuestros objetivos no son los mismos que los del gobierno de españa nuestra acción exterior es distinta

de chiringuitos cuando son las instituciones que sirven de nexo cultural y económico con las regiones y países comparables que sirven de apoyo a la internacionalización de las

eta amaitzeko respecto del euskera señor iturgaiz

y nos distingue del mundo porque por eso mismo nuestra labor es garantizar el futuro del euskera euskera

debemos impulsar a través de políticas activas y ahí está e i te be que es consecuencia de nuestras políticas lingüísticas

e i te be es el primer grupo de comunicación de euskadi y sigue aumentando su respaldo social crece en televisión radio e internet y es líder en informativos es nuestra cadena pública

pero nosotros el partido nacionalista vasco continuaremos trabajando para alcanzar las condiciones que faciliten el uso del euskera en todos los ámbitos reclamando la oficialidad del euskera en todas las instituciones internacionales

y la forma de ver la vida únicamente una administración que recorra junto a la sociedad el camino del bilingüismo será capaz de ofrecer un servicio avanzado y de calidad

egun on denoi nosotros no tenemos la misma visión

señor consejero nosotros sí pensamos que los presupuestos están diseñados en la misma lógica que en años

de continuistas pero sobre todo lo que pensamos es que responden a un modelo que no está siendo garantía para una distribución de los recursos públicos

en este país así como para garantizar la igualdad y la cohesión social que necesita euskadi más bien al contrario pensamos que se trata de unos presupuestos al servicio de un modelo que al final deja en manos privadas una parte de lo que es de todas y de todos

muchas veces de un modelo al dictado de los intereses de las élites no compartimos un modelo que pensamos que pone los recursos públicos al servicio de manera preferente del capital pero más allá de la retórica que como cada año acompaña a la presentación de los presupuestos un análisis pormenorizado de la ley revela un marco económico efectivamente continuista con la excepción

contra la crisis covid ante la magnitud del colapso económico experimentado este año dos mil veinte

de debilitamiento de servicios públicos como consecuencia de recortes y políticas austericidas de la derecha vemos que ha primado de nuevo

de dar una contundente respuesta pública a la crisis socioeconómica pospandémica la creación de esta

que ya ha dejado claro además el consejero que estamos hablando de hechos

para este ejercicio presupuestario se lleva todo el incremento del gasto presupuestario por lo tanto en nuestra opinión ningún impacto sobre las políticas ordinarias sobre el modelo del país van a continuar siendo las mismas políticas y nosotros no las compartimos esa partida especial supone además un grosero grado de discrecionalidad para el gobierno

presupuestario los presupuestos presentados este año conservan en nuestra opinión básicamente la misma lógica de trasvase de dinero público al sector privado que en años anteriores y mantienen además algunas medidas de recorte que fueron ideadas y puestas en marcha en la anterior crisis

es un modelo que sigue mimando las necesidades de la patronal y grandes empresas a través de distintos programas pero sin garantías

de los empleos y a la par destina una buena parte de los recursos económicos de los servicios públicos también para el sector privado una parte del cual una parte del cual en este país vive exclusivamente de nuestros servicios y recursos públicos además de las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadoras mientras tanto mantenemos la mayor tasa de temporalidad en el empleo público de todo el estado por lo tanto para nosotras es un modelo de gasto injusto y es también un modelo que se sustenta en unos ingresos injustos este modelo y estos presupuestos se sostienen sobre un modelo fiscal injusto que penaliza

capitalistas nosotros volvemos a denunciar lo hemos hecho otros años lo que para nosotros es

mezclar la negociación de fiscalidad y presupuestos cuando efectivamente fue la moneda de cambio con el partido popular en dos mil dieciocho dos mil diecinueve

tampoco es un problema de competencias son los mismos partidos quienes gobiernan en diputaciones y quienes gobiernan en euskadi y somos los mismos partidos quienes estamos en la oposición en ambas instituciones tampoco es un problema de tiempos llevamos cinco años escuchando al gobierno que no es el momento que hay que analizar

popular el problema seguramente es que no se quiere negociar fiscalidad con la izquierda porque tenemos modelos diferentes se debería ser honesto y decirse así con los presupuestos sí se está dispuestos a negociar algunas partidas y montantes pero no se está dispuestos por parte del gobierno a hablar de contenidos

porque son modelos diferentes nosotros hemos estado dispuestos a negociar en estos presupuestos es verdad pero creemos sinceramente que el gobierno no se nos convocó a una reunión

agotado el tiempo y en una cosa tenía razón el señor iturgaiz que ha intervenido antes estas cosas lo hemos comprobado también otros años comienzan antes y comienzan de otra manera cuando hay voluntad sin embargo aunque son modelos diferentes nosotros mantenemos que a pesar de los modelos diferentes cuando llegan las negociaciones

pero ha sido difícil porque como decía no se ha querido entrar a hablar de contenidos de modelo el consejero aseguraba en prensa posteriormente a estas negociaciones que tenemos que explicarle cuál es la diferencia de modelo que no la encuentra por eso a mí pues me gustaría tener ese aprecio y contestarle nosotros llevamos una plataforma negociadora que incluía

que ustedes rechazan un aumento del déficit que no comparten la puesta en marcha de la banca pública de la que supongo que no quieren oír hablar una empresa de energía pública

que no deben verla en cualquier caso estas son las razones por las que nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad y votaremos

egun on guztioi alguien se acuerda de consuelo landa

en euskadi aquel día yo creo que todos compartíamos el mismo sentimiento y era

y también la convicción de que desde luego íbamos a hablar mucho sobre la vacuna y vaya que si lo estamos haciendo pero no en el sentido que esperábamos

de sabas de vacunas privilegiadas de responsabilidades políticas que nadie asume lo que demuestra que es la constitución de una comisión de investigación en este parlamento que aclare todo lo que pasó que desde luego no fueron unos descontroles aislados sino fue algo arraigado mucho más profundo que tiene que ver con el abuso de poder y con la utilización de los privilegios de manera éticamente reprobable

de la oposición la misma oposición aprovecho ya para decirlo que ayer pidió de forma unánime la dimisión de la consejera de salud

bermatu ahal izateko sin embargo el proyecto que nos presenta el gobierno vasco

reto histórico pues es y se ha dicho varias veces es continuista es prácticamente idéntico al aprobado el pasado ejercicio con la excepción

diecinueve cuya cuantía también como apuntaba mi compañero de grupo

de partidas y programas que son preexistentes que han sido

de este programa si nos fijamos en los ingresos la caída de la actividad productiva se trasladará a una menor recaudación en el impuesto de sociedades que ya había reducido su recaudación en un doce por ciento por la inoportuna

y que consideramos que hay que revertir de la misma manera que hay que eliminar las ventajas fiscales que se conceden a instituciones y empresas financieras

a los de la inmensa mayoría de los hogares vascos

el gobierno vasco emitirá deuda pública sin embargo

inferior al quince por ciento pese a que los acuerdos de la comisión mixta del concierto económico sitúan el límite en el dieciséis coma nueve por ciento de la comunidad creemos que deberían agotarse esos márgenes posibles

tampoco se entiende la total ausencia de los ingresos que se esperan por los fondos europeos

ausencia en los presupuestos introduce como un marco de excepcionalidad en la gestión de los mismos es probable no sabemos que el gobierno vasco esté contando con cargar a las espaldas del estado precisamente y de los fondos europeos la recuperación si nos fijamos en los gastos

magnitud del colapso de dos mil veinte nos parece que ha primado la obsesión por el equilibrio fiscal

y necesaria a la crisis hablemos de salud la pandemia ha tenido su reflejo en un aumento del gasto sanitario parece poco probable que este presupuesto consiga amortiguar los efectos de la crisis sanitaria solventar el colapso de la atención primaria y revertir una década de recortes y

de contar o que haga posible contar con un sistema de salud público

como el que nos está planteando la pandemia la desregulación y privatización del sistema sanitario el deterioro de los derechos laborales el debilitamiento del modelo de atención primaria la falta de personal las desorbitadas tasas de temporalidad

de los trabajadores en la sanidad

que estén provocados por la pandemia son algunas consecuencias de las políticas de los últimos gobiernos en materia de sanidad pública y es que estamos muy lejos estamos a años luz de la media de inversión en sanidad del resto de los países de europa

de otros lugares creemos que hay que hacer un mayor esfuerzo presupuestario

y además un esfuerzo que no puede ir dirigido a cualquier sitio sino que un veinticinco por ciento de todo este esfuerzo debería dirigirse del gasto real de la sanidad debería dirigirse a la atención primaria porque así se evitarían sobrecargas sobrecostes

y evitaría la evolución y complicación de patologías

creemos que orientar los recursos a la gestión pública directa evita sobrecostes por la necesidad de obtener rentabilidad por parte de las empresas contratistas

hablemos de educación el sistema educativo se ha tenido también que adaptar

de pandemia y se ha hecho sobre todo a costa del esfuerzo del personal y del alumnado el presupuesto de educación no alcanza para ofrecer unos servicios de calidad que permita una bajada de ratios una reversión de la tasa de interinidad

infraestructuras de la red de centros públicos

apostar por la digitalización y la democratización de la enseñanza aprendizaje contando con una plataforma digital pública apostar por la universidad del país vasco euskal herriko unibertsitatea y por su personal investigador concretar

y apostar por políticas activas de igualdad en todo el departamento hay que revertir los recortes de los últimos diez años hasta alcanzar

en la actualidad estamos en el tres coma noventa y cinco por ciento incluso por debajo del cuatro coma dieciocho

hablemos del sistema público de cuidados y de igualdad

con la pandemia ha sido brutal y necesitamos un sistema que garantice que toda persona que lo necesite será atendida en condiciones

y que lo haga generando además que esto se haga generando un empleo

propuesto publificar residencias guarderías públicas gratuitas regularizar los servicios domiciliarios generar redes de apoyo comunitarias y que haya más equipamientos públicos

no contempla tampoco vemos en este presupuesto una estrategia que permita ampliar la protección de las mujeres y también de las identidades sexuales diversas frente a la discriminación y estructural y frente a las violencias

para emakunde es insuficiente para las tareas y las funciones que tiene encomendadas por la ley un año más asistimos también a la falta de concreción y de planificación real con perspectiva de género del conjunto de los presupuestos

es verdad que desde el gobierno se viene planteando que es necesario el impulso de políticas públicas con el objetivo del incremento de la natalidad por ejemplo pero digamos que las maternidades

el apoyo institucional suficiente y estos presupuestos no lo posibilitan hablemos de desarrollo económico y de transición ecológica el departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente transfiere más de la mitad del presupuesto a empresas públicas

los proyectos a los que se destinarán las inversiones para inversiones del propio departamento apenas quedan veintiocho millónes y las inversiones reales estarán en las empresas cuyos proyectos y gastos son muy difíciles de trazar y que además están liderados por cargos políticos

si nos fijamos por ejemplo también en el ente vasco de la energía continuismo se vuelve a invertir en shesa una empresa por cierto deficitaria por improductiva

y esto se contradice también con la declaración de emergencia climática del propio lehendakari y las resoluciones de este parlamento que apuestan por un cambio de modelo energético por eso por eso nosotras lo que proponemos desde elkarrekin podemos lo que proponemos es la creación de una empresa pública de energía que genere y comercialice energía

a lo oligopolio energético y a su manipulación de los precios de la energía por su parte la verdad es que la dirección del patrimonio natural y cambio climático tampoco apenas cuenta con fondos para restaurar y proteger los espacios naturales protegidos los cuales se encuentran presionados en este país por los usos agro ganaderos forestales

los presupuestos de la dirección de calidad ambiental siguen apostando también por mantener y no por aumentar ya lo dijimos en comisión la red de calidad del aire y no invierten en proyectos innovadores para controlar a tiempo real a las empresas contaminantes de nuestro país

tras la catástrofe de zaldibar solamente se invierte

última opción para europa vertederos e incineradoras y no se contempla avanzar hacia el residuo cero tal y como exige

hablemos de empleo respecto al empleo marcarse como meta una tasa de desempleo del diez por ciento es renunciar a lo que unos presupuestos

tener como impacto real los presupuestos a través de los presupuestos creemos que se debe garantizar que hay una inversión permanente de capital público

y con participación en la gestión en aquellas empresas que se consideran estratégicas y que se encuentren en peligro de cierre o

cada inversión o subvención pública a empresas debe requerir el mantenimiento de los puestos de trabajo a su vez creemos que hay que reforzar la plantilla de los servicios públicos

educación pública vasca inspección de trabajo osalan servicios municipales

urge la puesta en marcha de un plan de choque para garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para las empleadas de hogar y también creemos que es necesario un plan de rescate para autónomos y pymes con ayudas específicas para el turismo la cultura

hablemos de protección social la verdad es que causa perplejidad asistir a este

semejante crisis social que estamos viviendo y creemos que tenemos que desplegar un escudo social vasco ante el aumento de la brecha salarial el desempleo la precariedad la pobreza y la exclusión social que ha repercutido por cierto de manera especial como siempre sucede en los sectores más desfavorecidos

y lo que reflejan los presupuestos es que el plan es seguir como estamos

no se entiende que el gobierno no equipare la subida del rgi a la última subida del salario mínimo interprofesional y que se mantenga el recorte de dos mil once

en las ayudas de emergencia social o que no se despliegue una protección efectiva para la población que se ve afectada por la pobreza energética o el aumento de la pobreza infantil

que se mejore el sistema de servicios sociales que sigue sin completar su despliegue necesitamos invertir más y mejor para erradicar los cuellos de botella que se han identificado como la falta de acceso a la información

en las personas usuarias tampoco vemos el esfuerzo que debería haberse incluido

este parlamento viene reiterando la necesidad del despliegue integral y multidisciplinar del sistema vasco de acogida a personas migrantes y refugiadas

las políticas es necesario financiarlas y este presupuesto no responde a este reto

catorce años después de la aprobación de la ley de cooperación se sigue incumpliendo esta ley

a esta partida hablemos de vivienda el problema de los desahucios

en la actualidad además producto también de la crisis sanitaria los hogares cuyos ingresos han caído de forma significativa o sus miembros

corren riesgo cierto de perder su vivienda a pesar de la suspensión de los desahucios durante el estado de alarma pero estos presupuestos revelan que el gobierno vasco pospone un año más el desarrollo del derecho subjetivo

pero su propio ritmo de crecimiento y vinculado a un presupuesto insuficiente hace imperiosa que haya una intervención en el mercado privado y no se pueden avalar

en esta dirección hablemos de transporte también más continuismo el acuerdo de gobierno contempla la implantación del billete único pero estos presupuestos no contemplan partidas específicas para hacer eso posible en contraste con otras obras por cierto de dudosa sostenibilidad social y desde luego nula medioambiental como es la subfluvial de la ría de bilbao la supersur de bizkaia

en lugar de estas resulta que las líneas cuatro y cinco del metro de bilbao quedan relegadas una vez más

durante la pandemia creemos que es necesario aumentar el parque móvil de autobuses y el personal para poder aumentar las frecuencias y así favorecer las distancias mínimas de seguridad dentro de los vehículos

el gobierno ha reducido la plantilla de la administración pública en comparación con los niveles precrisis en muchos servicios públicos

incurriendo constantemente en fraude en la contratación

y de privatizarlos sistemáticamente y eso no significa otra cosa que empleo subcontratado en peores condiciones laborales

pocos empresarios nos encontramos también un año más con un elevadísimo gasto de recursos en licencias para sistemas y aplicaciones informativas privativas que son de uso restringido y de código cerrado y por tanto son por definición inseguras

sin coste de licencias que son más estables más seguras que las privativas el desarrollo del sector libre es condición necesaria para la soberanía tecnológica

y localizados hablemos de cultura el sector cultural es uno de los

que ya estaba precarizado y que encuentra como única respuesta

que hace el gobierno vasco y es que los incrementos que contempla el presupuesto son para los programas de deportes y política lingüística mientras que los programas de promoción cultural y patrimonio no sufren ningún incremento al contrario retroceden en su financiación en un cero coma siete por ciento y en un cinco por ciento respectivamente por eso nosotras

que otro modelo de política cultural que ponga a los creadores y a sus problemáticas en el centro de las medidas políticas es posible por eso

los planes de igualdad y la creación de planes de empleo específicos para este sector en conclusión el proyecto de presupuestos denota una visión de la crisis provocada por la pandemia como algo pasajero para lo que solo necesitamos un programa específico con el que atender una situación que es coyuntural

todo volverá a ser como antes por tanto más allá de este programa el presupuesto se deja prácticamente idéntico al del ejercicio anterior

y nada más pero ni siquiera explota todo el margen

negociado en el marco de la comisión mixta del concierto económico este presupuesto sigue siendo neoliberal sigue sin revertir los recortes realizados durante la crisis anterior no avanza en lo que se destina respecto a la riqueza generada

es ilusorio con las políticas específicas de igualdad mantiene los recortes en protección social y en la rgi y profundiza

externalización y en la precariedad ante esta realidad nosotras

una alternativa una alternativa que parte de la visión de las consecuencias de la crisis como profundos efectos sociales creemos que necesitamos unos presupuestos mucho más expansivos aprovechando la totalidad del margen del endeudamiento y realizando inversiones suficientes para atender a las necesidades derivadas de la crisis que es sanitaria

pero con modificaciones estructurales y no solo coyunturales necesitamos incrementar la inversión en sanidad pública hasta alcanzar la media europea

los comedores escolares necesitamos una plataforma educativa digital pública

y por su personal investigador necesitamos concretar la gratuidad de la educación de cero a tres años

que garantice que toda persona que lo necesite será atendida en condiciones con empleo no precarizado y

las residencias necesitamos también incrementar sustancialmente la inversión en políticas de igualdad

y las violencias machistas así como también para implementar de verdad en serio la perspectiva de género en los presupuestos

y que hay que crear una empresa pública de energía eléctrica que permita

y precios así como avanzar en la descarbonización y en la electrificación de los hogares

creemos que hay que aumentar el presupuesto de la red de calidad del aire para evitar que se produzcan nuevos episodios como el de zaldibar creemos que hay que reforzar la inspección de trabajo para luchar contra las horas extras ilegales y las muertes en accidentes de trabajo

creemos que es necesario complementar la prestación por falta de actividad para autónomos que hace el gobierno central pensamos

de emergencia social necesitamos creemos que necesitamos también la ampliación de parque

de alquiler asequible creemos también que hay que invertir en transporte público más para garantizar las distancias mínimas de seguridad dentro de los vehículos por todas estas razones creemos

alternativa y creemos que el proyecto de presupuestos que presenta el gobierno vasco

presidenta yo quisiera en primer lugar valorar el proceso de negociación

la actitud de este grupo planteando una propuesta de máximos y sin líneas

y de ahí que también resulte relevante la oferta del gobierno vasco que suponía un impacto de noventa y siete millónes de euros para poder influir en políticas de salud de cuidados de igualdad de violencia de género de protección e inclusión social de educación de empleo de medio ambiente y de eficiencia energética también me parece importante que se incluyera en la oferta del gobierno vasco el refuerzo de ciertas políticas y la aceleración de otras así como la inclusión de ciertos compromisos en ámbitos como la vivienda la economía la fiscalidad y la energía a los socialistas

porque suponía una capacidad de influencia del doce coma dos por ciento de incremento en el gasto real y además era una oferta viable enmarcada en las competencias del gobierno vasco

y acorde también con una mejora de determinadas partidas de gasto dirigidas a políticas públicas y acciones concretas con las que estábamos

pero bueno la negociación pasó y no fructificó y nos encontramos con esta enmienda a la totalidad y miren hay muchas formas

aparentar que un conejo sale de una chistera que un cuerpo puede partirse por la mitad sin que le pase nada a la persona que está en esa caja

de llegar a un acuerdo pero la magia es en definitiva un truco

que no han estado en los términos de la negociación remitidos al gobierno vasco

el pañuelo se han vuelto a aparecer los miedos al qué dirán qué van a decir y criticar los sindicatos que alguno además ya me estaba apretando el zapato y presionando

euskal herria bildu de nosotros qué pensará alguien dentro de cuatro años cuando haya nuevas elecciones en definitiva un miedo escénico y en este caso el vértigo político han optado desde elkarrekin podemos e izquierda unida por la táctica de aspirar a influir solo allí donde gobiernan o en navarra donde no gobiernan aunque sean momentos y circunstancias excepcionales no hacen el esfuerzo de priorizar apoyar o reforzar la protección a los más vulnerables

como un partido coherente y responsable o como partidos coherentes y responsables los socialistas podemos entender que para elkarrekin podemos el escenario

un tripartito que pregonaban sin contar con el criterio de quien era imprescindible el de los socialistas vascos y hacer tabla rasa de cualquier política de quienes les precedieron en estos escaños y de forma expresa por implicarse en acuerdos de fondo al señor hernández y también a su compañero

la coherencia por haber mantenido la posición de hace un año

de un lugar como es el parlamento donde día a día nos encontramos por los pasillos con la pluralidad del país al que representamos y con el peso además que tenemos cada cual pusieron sobre la mesa una declaración de intenciones querer negociar los presupuestos y el gobierno aceptó el envite y las negociaciones pueden prosperar o bien también pueden fracasar eso es natural lo llamativo es que dentro del fracaso ustedes sustenten una enmienda a la totalidad en términos que lo hacen y que complementan con enmiendas al articulado y a las partidas presupuestarias como si los consejeros y consejeras del gobierno vasco no hubieran pasado por este salón de plenos y no hubiesen respondido a las preguntas de forma oral y también de forma escrita

en este pleno tuviéramos que empezar otra vez la legislatura desde cero y no llevásemos trabajando meses en el parlamento vasco y en el gobierno y les pongo un ejemplo

los presupuestos plantean por primera vez desde el propio proyecto de presupuestos sin negociación con nadie no fruto de una negociación un incremento del doble de los salarios públicos bueno pues elkarrekin podemos e izquierda unida ni cuestionó ni valoró esto en la comparecencia

de la vicelehendakari segunda ni lo ha cuestionado en las preguntas que les ha hecho por escrito ni lo ha cuestionado ni valorado en la negociación con el gobierno vasco

ha pedido un incremento mayor para la renta de garantía de ingresos ni una décima más han pedido podían haberlo hecho pero no lo han hecho y los socialistas nos preguntamos si es posible

quieres o pretendes pactar no plantea sus propuestas con franqueza la pasada legislatura no hicimos el debate sobre el sistema de protección porque entre otros

dejó correr el tiempo para que no se pudieran presentar enmiendas pero tendremos ese debate esta legislatura y además no podrán ustedes hacer escapismo se puede hablar de fiscalidad claro que se puede hablar de fiscalidad cuando hablamos de presupuestos porque a todos nos importan a todos nos interesan los ingresos

y este gobierno y los partidos que lo sustentamos hemos dicho que vamos a hablar de fiscalidad tras la evaluación de las reformas realizadas en una coyuntura más propicia

ahora bien para los progresistas la fiscalidad no debiera ser una carrera de tipos impositivos eso es muy propio de las derechas pero no del discurso de las izquierdas

necesaria para conseguir y mantener los servicios públicos así como el apoyo a la actividad económica que queremos para nuestra sociedad por eso hay que definir qué queremos hay que definir cuánto cuesta hay que definir cómo se paga y así podremos establecer las normas tributarias más adecuadas

y los socialistas vascos llevamos muchos años planteando que nuestra voluntad en materia fiscal es caminar hacia una convergencia fiscal europea pero de momento no vamos por mal camino

vamos progresando y vamos caminando hacia la convergencia como el resto de españa porque aunque podemos haya decidido quedarse en esta batalla

unos que los quieren bajar mucho y otros que los quieren subir a tope sería bueno recordar que se acaba de aprobar en españa una subida del tipo real del impuesto de sociedades

el que realmente pagan las empresas al quince por ciento quince por ciento y en euskadi está en el diecisiete por ciento diecisiete por ciento esa es la reforma inoportuna señora gorrotxategi y si quieren quedarse en ese bucle

a los socialistas vascos en este momento lo que nos interesa es que las empresas sobre todo puedan pagar puedan contribuir pagando los impuestos que les corresponda activas y porque tienen beneficios y nos interesa que esos beneficios repercutan también en el salario de sus trabajadores y además en los servicios públicos no voy a entrar

le echan a esta enmienda a la totalidad por su falta de rigor porque no se atiene además a la verdad y porque es un calco a las ya planteadas y debatidas

de rigor porque mezclan entes públicos organismos autónomos sociedades públicas

a buena pluma de más ingresos sin decir cuánto ni por qué vía con números en la mano con cifras concretas lo que es además de llamativo recurrente por parte de su grupo desde que están en este parlamento las enmiendas a la totalidad del elkarrekin podemos izquierda unida que debatimos en la pasada legislatura eran

excepto por un término el de pandemia denostaban la política económica del gobierno como ahora

en el capítulo de gastos su última enmienda a la totalidad por ejemplo se estructuraba en cinco capítulos un presupuesto que no prioriza la lucha contra la desigualdad

para potenciar el empleo y el desarrollo económico un gobierno que refuerza un sistema educativo a dos velocidades una acción continuista en el resto de las áreas y un capítulo de conclusiones todos estos asuntos se solventaron y quedaron aparcados con un acuerdo presupuestario con elkarrekin podemos dos mil veinte el último año de la pasada legislatura y además un año electoral un acuerdo que tenía un impacto de ochenta millónes y ahora vuelven a las andadas

veintiuno y con una táctica para los acuerdos presupuestarios que solamente ustedes comprenden o entienden su coherencia respecto a lo que hacen allí donde gobiernan y además no se atienen a la verdad al decir que el empleo no es la prioridad del gobierno vasco en estos presupuestos cuando es el compromiso

de la página número uno del programa de gobierno y el empleo y la política de empleo está explicitada en la primera página del proyecto presupuestario y les falta sustrato cuando hablan de falta de apoyo a los autónomos cuando debieran saber que hay vías directas de apoyo al emprendimiento más de ocho millónes de euros en lanbide y más de tres millónes de euros son los presupuestos que hay en el departamento

política para los socialistas y del gobierno vasco las políticas de impulso al alquiler de viviendas con la ampliación del parque público de viviendas y las respuestas al derecho subjetivo a la vivienda ya adelantó además el consejero iñaki arriola en su comparecencia la construcción de mil doscientos cincuenta viviendas protegidas en alquiler y la captación

destinándose el setenta y cinco por ciento del presupuesto de vivienda y de sus sociedades públicas a gasto directo en políticas de alquiler y el veinticinco por ciento

y tampoco merece mucho la pena detenerme en hablar de lo que ustedes definen como falta de compromiso contra el fraude laboral cuando en cuatro años se han regularizado

y los presupuestos contemplan tres inspectores más y la creación de cuatro nuevas plazas qué entienden en elkarrekin podemos izquierda unida por falta de compromiso contra el fraude laboral cuando los presupuestos contemplan incrementar además las campañas contra el fraude y los planes de igualdad también faltan a la verdad

según los plazos que van marcando el propio ministerio de trabajo

y que aquí en euskadi cuenta además con un presupuesto específico para su divulgación junto a la campaña contra la brecha salarial además de programas específicos para que las mujeres se cualifiquen en sectores mejor remunerados estamos hablando de una consignación presupuestaria

a actuaciones que precisamente llevan el enunciado de lucha contra la brecha salarial inspecciones que garanticen la igualdad o el fomento del emprendimiento y el talento femenino

son partidas nuevas que no existían en los presupuestos de dos mil veinte estos presupuestos para dos mil veintiuno plantean también

y plan de acción contra la brecha salarial propone nociones específicas

cambios en el buzón contra el fraude para destacar las denuncias relacionadas con el control del fraude

tendrán continuidad las unidades de igualdad en las inspecciones de trabajo de araba

se plantea un programa piloto de elaboración de informes de impacto de género en la negociación colectiva con tres actuaciones la evaluación de la igualdad

y formación a la inspección de trabajo en materia de género y la constitución de un servicio para el análisis de impacto de género de cada convenio colectivo

un informe que ha de servir para que las comisiones negociadoras conozcan aspectos de contenidos no discriminatorios y fomente la igualdad

y solo me detengo un momento con los complementos de los erte antes de ayer

a propuesta de su presidenta que es la vicelehendakari segunda idoia mendia acordó su prórroga y en el proyecto presupuestario para dos mil veintiuno está la dotación económica que se precisa para esa prórroga y la forma en que se hace

con la patronal y con los sindicatos comisiones obreras y ugt y se lo hemos dicho muchas veces

y ahora más que nunca porque ustedes están también en otra mesa de diálogo social y la dirigen no hay mejor forma de avanzar que la concertación

están siendo un ejemplo para la política política que los socialistas echamos en falta en este debate presupuestario el compromiso

el de elkarrekin podemos e izquierda unida más allá de las diferencias por sacar a euskadi

oposizioak daukagun arduratasun politikoaz jabetu ez izana tal y como he comentado en mi anterior intervención el gobierno vasco ha negociado con todos los partidos políticos de esta cámara y en tiempo record el gobierno ha negociado para que partidos políticos con menor representación puedan plasmar sus propuestas en el proyecto presentado sin que ello implicarse obviamente la ruptura de nuestro modelo

y así ha sido con el grupo elkarrekin podemos con quienes ha habido una negociación sincera pero que tras varias reuniones ha culminado sin éxito y no señor hernández no fueron los últimos

para finales pero en cualquier caso desde el partido nacionalista vasco queremos agradecer al grupo de elkarrekin podemos

estamos seguros de que será un primer paso para conseguir apoyos en otras cuestiones es un buen camino a seguir y otros partidos políticos de esta cámara sin cronificarse en la oposición deberían seguir su ejemplo

de dejar los vértigos políticos a un lado porque tenemos enfrente unos presupuestos que incluyen un fuerte crecimiento en salud y educación no voy a repetir las cifras ya dadas en mi anterior intervención un programa covid dotado de quinientos cuarenta y dos millónes más inversión pública

y no solo eso el gasto social absorberá un setenta y siete coma ocho por ciento del presupuesto

para el cual el gobierno vasco ha elaborado el documento euskadi next una respuesta local para afrontar un reto global programa de inversiones que aspira a recibir fondos europeos por valor de cinco mil setecientos millónes que sean capaces de activar

millónes de euros programa que ha recibido aportaciones de diferentes agentes sociales económicos e institucionales hablamos por lo tanto de proyectos contrastados bajo el paraguas de un modelo participativo

con interlocutores y agentes sociales para la implementación exitosa de los planes de recuperación y resiliencia y así lo ha hecho el gobierno vasco

y con la transparencia debida ante este parlamento a través de numerosas comparecencias incluso un pleno monográfico y así lo seguirá haciendo con su compromiso plasmado en este proyecto de presupuestos para dar cuenta trimestralmente de la evolución de los fondos europeos

y digo que es un ejemplo más para vincularlo a una mención del grupo elkarrekin podemos en su enmienda ya que dicha transparencia se traslada a todas las sociedades públicas fundaciones

todas transparencia en los presupuestos de sus entes y sus liquidaciones presentadas ante este parlamento resulta paradójico

cuando su función está siendo tan relevante en la internacionalización del tejido empresarial vasco

cuatro jornadas de trabajo maratoniano intenso y honesto tres

noventa y siete millónes de euros para poder influir en políticas de salud veintitrés millónes para reforzar la atención primaria y para inversiones en osakidetza a cuidados igualdad y violencia de género tres coma cuatro millónes a educación

ocho coma cinco millónes para la prestación complementaria de vivienda cuarenta y seis millónes para empleo ampliando las ayudas del gobierno vasco sobre los erte

en medio ambiente y eficiencia energética siete millónes de euros incluyendo el fomento de energías renovables y autoconsumo y el programa de rehabilitación energética de edificios propuestas que suponen que el grupo elkarrekin podemos pudiera influir en el doce por ciento del incremento del gasto real

ustedes han reconocido el esfuerzo dinerario sabiendo que aritméticamente según sus propias palabras no son necesarios pero el gobierno ha ido más allá y ha hecho un esfuerzo por ofrecer al grupo elkarrekin podemos compromisos de índole más política

apoyos más amplios incluyendo para ello propuestas en los ámbitos como la vivienda en materia de economíay fiscalidad planteando un debate sobre la reforma fiscal por tanto sí señor hernández más allá y en el ámbito energético ofreciendo por ejemplo el compromiso de no realizar

cuando ustedes las formaciones que integran elkarrekin podemos han agradecido y reconocido el esfuerzo realizado por el gobierno vasco por recoger ámbitos que para ustedes son importantes como la vivienda en la que el gobierno vasco les proponía a poner en marcha un sistema de control de precios de alquiler que por cierto sí lo han aceptado cara a los presupuestos del ayuntamiento de vitoria gasteiz

y la creación de impuestos verdes pero aquí dicen ustedes que el mismo compromiso que les ofrece el gobierno vasco tiene un valor ínfimo

mi asombro tras constatar que ustedes iban a presentar una enmienda a la totalidad no ha sido excesivo ya que llevan varios meses lanzando proclamas en aras a ir su posición del no frente a estos presupuestos eta horrela esaten zuen hernández jaunak

horretarako jarrera gregarioak alde batera utzi behar dira eta cuando uno quiere pactar algo no utiliza un lenguaje de trinchera adelantando acontecimientos desde la posesión absoluta de la verdad cuando uno quiere pactar no se asusta cuando le ofrecen una oferta que avanza en aspectos que uno está reclamando hasta el punto de no querer analizarla

la decisión del no era previa a la negociación edozein kasutan datuekin azalduko dizuet zergatik diren aurrekontu hauek ausartak eta sozialak

a los del ejercicio dos mil veinte casi ocho de cada diez euros se destinan a salud educación empleo y políticas sociales

de veintinueve millónes de euros que incluyen quince millónes de euros más para ayudas de emergencia social seis coma seis millónes adicionales para subvenciones del fondo inor atzean utzi gabe la rgi y la prestación complementaria de vivienda

le recuerdo siendo un derecho subjetivo no se limita a su dotación gehiago

esfuerzo para mejorar la productividad en las listas de espera siete coma cinco millónes

la creación de nuevas plazas tres coma cuatro millónes inversiones por importe de veintiuno millónes de euros

de ciento seis millónes de euros trabajo por el empleo de calidad

se continuará trabajando contra la brecha salarial destinando uno coma cinco millónes contra la citada brecha salarial para inspecciones que garanticen la igualdad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

un refuerzo del enfoque interseccional de la lucha por la igualdad

cuestionar que el empleo no es la prioridad del gobierno es no haberse leído la primera página de berpiztu la primera página del programa de gobierno y la primera página de estos presupuestos

ocho coma tres millónes de euros al emprendimiento al complemento de los erte estableciendo

más recursos para la inspección de trabajo y el incremento de las campañas contra el fraude planes para reducir la temporalidad y la parcialidad planes locales y comarcales de empleo

hacia un modelo de relaciones laborales inclusivo participativo seguimos con la interinidad se reducirá también la alta interinidad del empleo público y ahí comparto su reflexión

la ley de cuerpos y escalas que allanará la estabilidad de los empleos públicos los cuidados la necesidad de poner el cuidado en el centro

y asimismo la necesidad de valorar los cuidados y repartirlos equitativamente

agenda dos mil treinta y en el plan de igualdad de euskadi y ese es nuestro objetivo y para caminar por esta senda se prevé en este presupuesto la extensión del servicio betion de teleasistencia la promoción de elkarrekin zaintzen con tres proyectos clave el polo transfronterizo de innovación

y el impulso de ecosistemas locales de cuidados sociales y sanitarios y sigo más en materia de igualdad y protección a las mujeres

son lo importante y las mujeres están en este eje para ello en este presupuesto dos mil veintiuno las subvenciones destinadas a las asociaciones de mujeres se doblan se impulsan los programas de prevención de la violencia contra las mujeres hasta trescientos mil euros

y podría seguir pero como cifra de cierre sí que me gusta decir que

al menos el nueve coma diez por ciento de este presupuesto se va a destinar a la perspectiva de género

eta amaitzeko ingurumena en medio ambiente con nuestro acuerdo por el clima el basque green deal con treinta acciones y para hechos recientes el plan de prevención y gestión de residuos

que supondrá una inversión de noventa y siete millónes de euros siendo su objetivo reconvertir un ochenta y cinco por ciento de los residuos no peligrosos en recursos secundarios y reducir a menos del quince por ciento

y a futuro con ayudas a las empresas para aumentar el reciclaje un canon para desincentivar el vertido y aumentar y mejorar la calidad de inspección y control ambiental

cuyos proyectos están orientados a la transición energético ecológica en un sesenta y tres por ciento

con un veintiuno por ciento un punto superior a lo marcado por europa beraz

eta irakurriko dizuet el programa de compra y contratación pública verde del gobierno vasco que ha logrado enverdecer cuarenta y seis por ciento de las compras de treinta y ocho organismos premiada a nivel mundial

reconoce al ejecutivo de euskadi como mejor administración en este campo hau da gure eredua

todos estos objetivos y las dotaciones presupuestarias son ampliamente coincidentes con sus objetivos ikusten duzuenez

porque hoy ha quedado sobradamente demostrado que son unos presupuestos valientes y también gracias entre otras acciones y planes a estos presupuestos euskadi es una sociedad con menos desigualdad y de las regiones europeas con menor tasa de pobreza madrid per cápita mayor es más desigual si bien debemos seguir avanzando y tal y como tenemos plasmado en nuestros objetivos de país

menos desigualdad para alcanzar estas tasas la rgi tiene un papel fundamental

del uno coma ocho por ciento un aumento progresivo y constante históricamente

no contributivas en el estado cómo se justifica su crítica

pero además ustedes han defendido en las cortes generales que lo importante del ingreso mínimo vital es su valor protector y no su cuantía

luego es curioso que en esta ocasión y aquí su valor protector

apostamos por una política para luchar contra las bolsas de pobreza y tratar de eliminar la desigualdad política que manteníamos en mil novecientos ochenta y nueve y que seguimos manteniendo

señora gorrotxategi les corresponden por competencias

el ingreso mínimo vital el mercado laboral y su reconversión lo mismo con los precios de la energía

no confunda los planos señora gorrotxategi ustedes mismos tienen la tarea para avanzar y no lo dude

para ello contamos con estos presupuestos de euskadi que son más expansivos que los apoyados por ustedes en dos mil veinte y más sociales que los presentados por ustedes este dos mil veintiuno en el estado ustedes comprenderán mi asombro y más aún cuando su postura contrasta con la iniciativa presentada por ustedes el pasado septiembre el veintidós de septiembre de dos mil veinte en esta cámara

a apoyar los presupuestos generales del estado ustedes nos solicitan que apoyemos sus presupuestos estatales

no los aceptan incluso con una propuesta de mejoras muy sociales y comprometidas con el medio ambiente con un claro encaje

muchas gracias por las explicaciones señor consejero empezando por algún sitio

hace mención a la magia y la vez habla de reformas fiscales en fin

en el ilusionismo en materia fiscal teniendo en cuenta que usted afirma que van en la dirección de la justicia fiscal a la vez que euskadi

a la vez que madrid y es difícil hablar de justicia fiscal cuando

en los tramos más altos y es verdad no es una cuestión de tipos no solo es una cuestión de tipos es una cuestión también de ingeniería fiscal y en este caso ese

nos encontramos en los tramos más altos y ahí es donde radican

no sé qué tiene eso de concertación en términos fiscales para alcanzar objetivos en justicia fiscal acordar con el partido popular y ahora también con ciudadanos en materia fiscal de hecho el partido popular ha hecho mención a las reformas fiscales y a la necesidad de reformas fiscales sí y sería oportuno y al consejero se lo he mencionado más de una vez en comisión que aclarara en qué dirección

dice que en la negociación se nos planteó la oportunidad de negociar o de hablar en relación con la reforma fiscal sí exactamente igual

marca que se va a efectuar una reforma fiscal de cara al dos mil veintiuno

que íbamos a abordar un proceso de conversaciones en el marco de un acuerdo que ustedes ya han adoptado en el acuerdo de gobierno ya ve usted lo que nos conceden absolutamente nada en términos de reforma fiscal

no que hablen con nosotros cuando llegue el momento en relación con la reforma fiscal bueno hablemos del marco negociador cuatro días

tiempo récord un período de negociación en tiempo récord sí sí ha utilizado esa expresión tiempo record ni en una junta de vecinos se llega a un acuerdo en cuatro días es complicadísimo alcanzar un acuerdo en un presupuesto de doce mil millónes

teniendo en cuenta además y ahí es donde existe la falta de compromiso que ustedes

en el sentido de que nuestra formación política alcanzó un acuerdo con ustedes en el dos mil veinte sí

meses en contestar en relación con el cumplimiento del acuerdo del dos mil veinte con nuestra formación política posteriormente una vez contestaron

en relación con el acuerdo presupuestario del dos mil veinte nada ninguna contestación en esa materia cuando hablan de noventa y siete millónes en el proceso negociador cuántos de ellos no son más que compromisos adquiridos en el dos mil veinte e incumplidos saben perfectamente que una buena cifra de esos noventa y siete millónes se tratan de acuerdos presupuestarios adoptados en el dos mil veinte que no han cumplido y lo que han hecho es

en lo que ustedes manifestaban en el dos mil veinte en relación con los presupuestos porque ahora son según ustedes

porque ni siquiera roza la tasa de referencia pactada en la comisión mixta cómo es posible que en un momento de economía de guerra prácticamente en un momento de pandemia no se alcance ni siquiera la tasa de referencia para endeudarnos y hacer uso del mayor gasto público posible

que es previsible teniendo en cuenta las olas que se están produciendo en relación con el covid es previsible que desde luego desde el sector privado no haya esa recuperación y ustedes sí lo apuestan a la recuperación desde el sector privado pero es que además incluso en el marco de las ayudas se denota

la economía en este país la mayoría de las ayudas que presta el gobierno vasco son avales son avales

avalando por parte del gobierno vasco esas ayudas y eso es nada menos que intentar poner en el sector privado el salvavidas de la economía a medio plazo y desde nuestra consideración no va a ser posible previsiblemente no va a ser

en el futuro pero el marco negociador no es que venga solo en relación con los presupuestos del dos mil veintiuno ya

denunciamos la actitud del gobierno vasco en relación con los acuerdos relativos a los fondos europeos de sesenta y seis propuestas que hicimos en un pleno monográfico no se aprobó ninguna pero además es que el periodo de negociación

se nos dijo tres días antes en un fin de semana que nos íbamos a intercambiar

al último momento en el pleno monográfico hablando de sesenta y seis resoluciones por nuestra parte y obviamente no se alcanzó ningún acuerdo porque no había ninguna intención de alcanzar ningún acuerdo por parte del gobierno vasco o en este caso por parte de los partidos que sustentan al gobierno vasco

en relación con los fondos europeos pero también en relación con el presupuesto de dos mil veintiuno pretendiendo que nosotros adoptáramos una decisión de responsabilidad en el último momento aceptando

en relación con los fondos europeos fuimos a un pleno monográfico fruto de la acción de la oposición

también fuimos a una comisión a una comisión a dar cuenta

en relación con este asunto fuimos a una comisión en la que el gobierno vasco expresó muy poco de nuevo en relación con los fondos europeos y con el tema de los presupuestos estamos exactamente en el mismo escenario hemos ido a un proceso negociador

con la que se alcanzó un acuerdo en el dos mil veinte a cuatro días vista para alcanzar un acuerdo yo permítame que le diga que yo creo que ustedes pensaban que nosotros no teníamos disposición de acuerdo

pero se produjo el acuerdo de gasteiz de vitoria y creemos que

no tienen vértigo igual sí que es posible que pacten desde la oposición

y entonces por paralelismo tendrán disposición

dos meses negociando nosotros en cuatro días pues cuando se alcanzó el acuerdo en gasteiz dijeron

que ustedes nos achacan y sí que hubiesen podido alcanzar un acuerdo al final obviamente por los tiempos

que superaran los movimientos de partidas en muchos casos como le decía antes compromisos incumplidos del dos mil veinte por la incapacidad de adquirir compromisos más allá de ese marco pues no fue posible

porque más allá de las palabras bonitas del inicio de sus intervenciones creo que después ustedes han hecho una crítica feroz

de nuestra formación política en relación con el proceso negociador que creemos que es sinceramente bastante injusta nosotros sí fuimos con

fue traducida a una contrapropuesta que de nuestra propuesta inicial contenía muy poco

negociadora creemos que lo que no ha habido es compromiso por parte del gobierno vasco para intentar negociar mucho antes y también aclarar ciertas cuestiones que estaban encima de la mesa como los incumplimientos del dos mil veinte

un plan de empleo garantizado que permitiese sostener las demanda agregada interna también

pretende hacerlo también que aplicáramos cierta imaginación política salirnos de fórmulas gastadas

de nuestro país como sucedió con los fondos europeos

pero consideramos que era fundamental plantear nuestra alternativa y a través

como lo hemos planteado en cualquier caso nosotros y nosotras sí que les tendemos la mano sincera a que podamos alcanzar acuerdos pero con los márgenes de tiempo necesarios con el grado de sinceridad también necesario y a partir de ahí seguramente podremos entendernos pero desde luego no digan que este proceso en tiempo récord ha sido una apuesta decidida por parte del gobierno vasco para alcanzar acuerdos porque por nuestra parte

gracias presidenta mire señor soto los socialistas vascos lamentamos la vuelta

la legitimidad de la discrepancia se puede entender también la crítica política y el posicionamiento contrario incluso a unas cuentas cómo no

pero los socialistas vascos no podemos entender que en un momento tan excepcional se priorice por elkarrekin podemos izquierda unida la estrategia política y partidista con una banal justificación de incumplimiento de acuerdos

de tachar estos presupuestos por su base continuista cuando fue precisamente elkarrekin podemos quien en base al acuerdo presupuestario apoyó los presupuestos para euskadi

justificando ese apoyo a los presupuestos de dos mil veinte y cuando el coronavirus no era más que una noticia muy incipiente y marginal en los medios de comunicación

no hay duda de que vivimos un momento en el que la manera en que afrontemos los retos globales y los retos propios pondrán las bases de la euskadi del futuro por lo tanto la política vasca se enfrenta al mismo dilema que la política global

o avanzar inmovilismo o impulso y las fuerzas políticas deben decidir qué postura deben adoptar en la construcción del futuro bien quedarse al margen confrontando y constatando el fracaso de cualquier decisión y política con la que no se esté de acuerdo o bien

desarrollando propuestas para modelar el futuro desde los principios que se defienden y lamentamos los socialistas vascos

no haya sido una decisión proactiva y colaborativa con estos presupuestos dos mil veintiuno los socialistas vascos pensamos que el esfuerzo realizado por el gobierno vasco en esa negociación presupuestaria

ha ofrecido mejoras ha ofrecido nuevas partidas económicas en salud en cuidados a las personas en igualdad en violencia de género en educación en vivienda

en protección e inclusión social un acuerdo presupuestario con un impacto para dos mil veintiuno de ochenta y nueve millónes de euros y además otro tipo de compromisos

dentro de nuestro ámbito competencial y todo ello ese esfuerzo era para lograr más apoyos unos apoyos más amplios en este momento

aun no necesitando numéricamente más apoyos que los que otorga la mayoría absoluta de los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos y lo hemos intentado

con valentía y además con intensidad porque creemos verdaderamente que nos encontramos ante esa situación tan excepcional que hubiera requerido de más altura de miras

así que los socialistas no vamos a lamentarnos más y como no hay tiempo que perder hoy rechazamos la enmienda a la totalidad de elkarrekin podemos izquierda unida para que continúe la tramitación de estas cuentas para dos mil veintiuno porque lo importante para los socialistas vascos es que estos presupuestos nos permitan encarar este recién iniciado dos mil veintiuno con esa fuerza y base política y económica suficiente

a la crisis económica y sanitaria generada por esta pandemia para asentar el presente

y estabilidad institucional y presupuestaria estos presupuestos son el camino para esa reconstrucción social y para la reactivación económica y del empleo en euskadi sin dejar

decía usted señor soto que los ilusionistas debemos de ser los socialistas vascos para nada para nada mire ustedes no han aportado en la legislatura pasada

cuando han podido influir en la reforma fiscal y en el debate monográfico sobre el tema fiscal y la fiscalidad que tratamos en este pleno en la legislatura pasada porque la oposición tenía mayoría y podía haber influido en ese pleno y no lo hicieron no lo hicieron así que la responsabilidad

es suya era suya no supieron influir ni llegar a acuerdos por lo tanto no valen lamentaciones y no valen quejas ni victimismos falsos segundo lugar

hasta en un pleno de control en el que el lehendakari dijo aquí cuáles eran los cumplimientos razonable cumplimiento

en los presupuestos para dos mil veinte con su grupo parlamentario

a sus inquietudes e incluso en la reunión que mantuvo con su coalición política por su grupo político oiga deje ya también de lamentarse

siempre de los demás también algo habrán tenido ustedes de responsabilidad por lo tanto y en cuanto a la tasa máxima de referencia y acabo presidenta

porque esto no acaba aquí los presupuestos y la legislatura no empieza y acaba hoy con este tema de las enmiendas a la actualidad quedan cuatro años de desarrollo de legislatura va a tener muchas consecuencias llegar a este máximo que hemos llegado de endeudamiento planteado en los presupuestos queda mucho tiempo

a lo que hoy estemos decidiendo por eso yo les pedía responsabilidad y altura de miras porque vale jugar bien allá donde se gobierna pero también es muy importante

de ahí que los socialistas vascos les hubiesemos pedido responsabilidad

lo principal es que la política es el arte de lo posible y en segundo lugar es que tienes que aceptar tu posición relativa

donde haciendo uso de nuestra posición alcanzamos acuerdos para mejorar el bienestar de euskadi

en cambio en euskadi nos encontramos con una oposición que no hace uso de su posición relativa

ya dijeron ustedes que el partido nacionalista vasco era la derecha casposa es ser de derechas haber impulsado el sistema de acción social más profundo del estado español

ayudas de conciliación acogida emigrantes a vivienda social la educación la sanidad pública e igualdad de género creo que deben redefinir su concepción del partido nacionalista vasco

en qué partidos confía y decidió también el peso parlamentario de cada uno de nosotros los números cantan y tratar de descalificar al partido con más representación de esta cámara implica descalificar a la ciudadanía vasca que ha depositado su confianza en nosotros

un pilar propio que considero que ha de tener la política el respeto

corremos riesgo de dar paso a derivas totalitarias y peligrosas no sé si son estos presupuestos son neoliberales

un año muy complicado que lamentablemente seguirá marcado por la covid y sus consecuencias sanitarias económicas y sociales

la reactivación económica y empleo reforzarán todas nuestras políticas públicas sin retrocesos ni recortes sino con más inversión y más gasto

elaborados en cuatro meses siendo lo habitual seis y negociados con sinceridad se requieren dos meses de negociación pues nos vamos a la investidura del señor lehendakari

las propuestas y la voluntad es lo que tienen valor y es lo que el gobierno vasco ha hecho propuestas claras que encajan en su modelo político

simplemente decirle que se cumplieron y se contestaron en tiempo y forma y plazo

por tanto no lo usen de excusa ante su postura inmovilista tenemos un entorno económico inestable consecuencia de la covid una situación de la política exterior enrarecida muchos factores y actores

de dar estabilidad política certidumbre y serenidad estabilidad política como valor para dar tranquilidad a la gente

y serenidad en el sentido de hacer un diagnóstico de la realidad con sosiego siendo conscientes todas y todos de la situación que vivimos

un presupuesto que con una voluntad política podría haber sido avalado por la práctica totalidad de esta cámara saben ustedes que son unos presupuestos razonables económica y socialmente que podrían haber sido ajustados con una clara voluntad política y altura de miras en su justificación afirman que el gobierno vasco no ha alcanzado los límites de déficit y deuda

y exigen agotar dichos límites si fueran algo más precisos en el cálculo partiendo de la base de que el pib de euskadi se sitúa en

pero eso sí recurrir a este endeudamiento señoras y señores de elkarrekin podemos no es un parche

más aún a la protección social sanidad y educación lo que no somos es dogmáticos de austeridad ni asfixia de austeridad ni exceso en endeudamiento si no miren cómo está japón

nosotros sabemos qué país queremos un proyecto de país que lo necesita ya

reducir el paro por debajo del diez por ciento superar el cuarenta por ciento del pib en la industria y servicios avanzados

colocar a euskadi entre los cinco países europeos con menor desigualdad social posicionar a euskadi entre los seis países europeos con mayor índice de igualdad de género consolidar la tasa de abandono escolar por debajo del siete por ciento y avanzar en el conocimiento y uso del euskera

reducir en un treinta por ciento la emisión de gases de efecto invernadero lograr que la cuota de energías renovables represente el veinte por ciento del consumo final de energía

las tasas de natalidad ese es nuestro proyecto de país pero no solo endeudamiento exigen al gobierno vasco

primero las revisiones fiscales se efectúan en función de la coyuntura económica que obviamente no es la misma en dos mil dieciocho y en dos mil veinte

política fiscal a seguir en la actual crisis de la covid que avala la postura del gobierno vasco y segundo

y a hacer una reflexión meditada sobre la reforma fiscal pendiente adecuada a la nueva realidad y orientada a una mayor progresividad

incluyendo los criterios medio ambientales pero tal es la relevancia que manifiestan ustedes sobre una revisión fiscal que cuando se les ofreció a su grupo en la negociación de estos presupuestos lo rechazaron y no solo eso es que el modelo fiscal que aplican en euskadi siendo oposición y el modelo fiscal que proponen en españa siendo parte del gobierno es bien diferente aquí proponen subir el irpf más aún que en euskadi más aún cuando tras navarra en euskadi

o subir el tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades cuando aquí ya contamos con un mecanismo para que el tipo efectivo se equipare al tipo nominal y en españa ni siquiera lo proponen o en navarra

lo que el gobierno vasco ofrece a su grupo en la negociación de los presupuestos de euskadi y aquí no lo aceptan se pueden plantear discursos tan distintos en función de donde está sentado

nuestro objetivo siempre ha sido el mismo aquí en madrid y en europa no cambiamos en esta crisis nuestro objetivo ha sido mantener abierto el país porque lo que quiere la hostelería el comer que las agencias de viajes es trabajar

presencialmente y esa ha sido nuestra apuesta siempre manteniendo un equilibrio entre la salud lo social y la economía y cuando no ha sido posible hemos apoyado y lo seguiremos haciendo a los sectores más afectados como ejemplo el nuevo programa de apoyo financiero a pymes y autónomos un programa estímulos a diversos sectores por valor de quince miles de euros y estas más esta misma semana se ha dado a conocer las medidas de apoyo dirigidas al sector turístico

y un nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca y lo mismo en la apuesta a los sectores estratégicos como nosotros siempre lo hemos hecho

el partido nacionalista vasco apostó por ella y así nos encontramos ahora entre las regiones más industrializadas la situación es difícil y seguiremos apoyando a la industria vasca badaukagu baliabideak sector estratégico honetan egoteko

y no no es buen animal abundar en el contrasentido es simplemente el sustrato ético de cada comportamiento y se puede ser revolucionario pero dejando a un lado el tiempo del ruido

a la presidencia de la república le preguntaron en noviembre sobre su postura ante la pandemia y la gestión del gobierno de macron contestó lo siguiente

de los que no estamos de acuerdo sobre cómo se gestiona la crisis se complica porque no podemos apelar a la desobediencia de la protesta

fuente de la toma de conciencia anticapitalista y ecologista hoy

eso no excluye el conflicto pero lo pone en segundo plano la idea es ser un factor de orden en lugar de un factor de desorden

hay que dejar a un lado la bronca permanente la protesta por la protesta el querer hacer daño con cualquier desgracia o eso reprobable

lo quieren conseguir con la pandemia pero nosotros a lo nuestro con una apuesta clara por la salud en estos presupuestos beraz amaitzeko todos estamos cansados de la pandemia y los profesionales de osakidetza también veo su preocupación

incertidumbre y estrés por tanto considerando todo lo anterior

la idea es ser un factor de orden en lugar de ser un factor de desorden

unión y consenso frente a la destrucción respeto hori da bidea eskerrik asko

ya lo señalábamos en septiembre cuando se iba a conformar este gobierno nunca antes

y por eso necesitan recibir respuestas firmes

este gobierno la de ofrecer certezas la de proteger y la de cuidar a las personas uste dut ez genukeela bistatik galdu behar jendea

políticas públicas equivocadas pueden incitar a la sociedad a una batalla de todos contra todos en busca de un salvavidas individual

por las vacunas también se puede con políticas acertar renovar y reforzar un pacto de apoyo mutuo que genere comunidad esto último

a usar los recursos colectivos para proteger a todas y cada una de las personas porque señor azpiazu no lo olvide usted nos lo dijo

orain da unea pandemiaren osteko politikak erabakitzeko nos estamos jugando mucho estamos en una encrucijada como sociedad

de estos presupuestos pero sobre todo va a venir de las decisiones estratégicas que tomemos y que pueden hacer que el futuro se dibuje en otras condiciones

deberíamos ser capaces de dialogar y de llegar a acuerdos mínimos sí acuerdos políticos hori da zehazki gure proposamenarekin eskaintzen genuena

horiek baitira euskal herria bilduren ustez egin beharreko ariketa horren hiru zutabeak un ejercicio inaplazable que no olvida que las cosas no iban tan bien antes de la pandemia la covid efectivamente

pero antes de la pandemia muchos de los indicadores esenciales o elementales en la cohesión presentaban valores preocupantes como los datos referidos a la precariedad

señales de una recuperación ineficiente de la crisis anterior con cáritas advirtiendo del riesgo de una sociedad que se rompía en sus bases

advirtiendo de la progresiva desaparición de la clase media fruto de un proceso de concentración de la riqueza en las capas altas de la sociedad con reparto

que condena a amplios sectores sociales a lo que podríamos llamar de crecimiento

una progresiva reducción de expectativas o dicho de otra manera el conformarse cada vez con menos en lugar de reajustar los mecanismos de reparto de la riqueza los instrumentos de legitimación del sistema nos empujan a evaluar

nuestras expectativas desde la resignación y el conformismo ahora el objetivo es el mileurismo o

del diez por ciento este gobierno ha sido y es un esforzado defensor del decrecimiento aspiracional

al cambio de tendencias para este gobierno nunca toca enfrentarse a la codicia de la patronal ni reformar la fiscalidad para

eta ez dakit bietako zein den okerragoa pero la realidad es muy tozuda y muy cruda y podríamos decir

que el gobierno ha plasmado en este proyecto de presupuestos el gobierno ha presentado unos presupuestos ordinarios para una situación extraordinaria la exposición del consejero azpiazu de hoy lo deja claro una exposición plana casi tecnócrata de las partidas que recoge este presupuesto

berdina da un proyecto ambicioso orainaldiaren

que ya ha sido superado por la realidad un presupuesto pensado

pero los datos demuestran que lamentablemente la crisis sanitaria y sus consecuencias

alargar y por tanto deberíamos disponer de un presupuesto acorde con esa realidad este proyecto de presupuestos se construyó sobre la idea de que la tormenta pasaría

el propio consejero azpiazu en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por nuestro grupo

provocados por la pandemia inicialmente para los primeros meses del ejercicio preveía este gobierno que tendría que afrontar una ola de las dimensiones de la que estamos viviendo peor que la de otoño pues a la vista del presupuesto está claro que no

va a ir mal no significa desearlo esto no va de cuanto peor mejor sino de señalar la necesidad de anticiparse para evitarlo o atenuar sus consecuencias pintar un arcoíris que ponga que todo va a ir bien pues puede ser muy motivador pero no vale para un gobierno que está obligado a la prospectiva a la anticipación pensar que algo va a suceder solo por desearlo pues es

no contemplan la posibilidad de la situación que estamos viviendo no lo contemplan la resaca de esta ola ha arrastrado ya este presupuesto antes de ser aprobado por partidas vemos que osasun arloan adibidez

y parece difícil que se pueda cumplir con eso que manifestó la propia consejera de poder retomar aquellos proyectos que se han ralentizado y las actuaciones

en las uci superará el máximo de la ola de otoño galdera da

ezetz y ya son tres los grandes hospitales vascos que se han visto obligados a suspender operaciones

la propia consejera reconocía recientemente que la presión se nota en todos los hospitales y entendía que la situación era a la vez de riesgo y de incertidumbre y el presupuesto no ofrece respuestas a ese tipo de situaciones

un esfuerzo insuficiente que en este proyecto ha desaparecido

han llegado a pie a esta sesión y habrán visto cuántos locales se encuentran cerrados muchos de ellos no van a volver a abrir sus puertas sería mejor en este caso

que el presupuesto se prorrogara deigarria da

adelantar que la situación antes del verano se fuera a aliviar ah no entonces por qué en estos presupuestos un dato de ayer el cincuenta y nueve por ciento de las solicitudes de las ayudas planteadas en el anterior cierre no se han cobrado

itxuraz ostalaritza turismo edo merkataritzako krisia amaitutzat eman du jaurlaritzak parece que el gobierno ha decidido externalizar el coste de la pandemia entre otros entre los hosteleros azalduko diozue hori ostalariei

con una cobertura de entorno a cinco mil trabajadores trabajadoras lejos

por cierto un nuevo fracaso más en una larga lista de ayudas que nunca llegaron y cuando la incertidumbre gana enteros en araba gipuzkoa y bizkaia de poder modificarla con celeridad nuestro sistema

como han hecho otros países de eso ni hablamos bueno igual sí si es para mantener los recortes para eso sí porque este presupuesto

en la renta de garantía de ingresos pues que sepan que oxfam hablaba

vascos y vascas que están ahora en más digamos veintiocho mil más que van a estar en situación de pobreza pisua galtzen dute aurrekontu hauetan

no nos plantean recuperar posiciones hacia los países que están en primera división sino aquí también conformarnos con llegar a la media

behin behinean bada ere ustedes que han sido más papistas que el papa en este sentido ahora nos lo venden

esta es la clave la percepción de lo que es necesario esa percepción de lo que es necesario el gobierno está en si hay necesidad

son tan acuciantes son tan evidentes tan urgentes y creo que sinceramente la ciudadanía también lo piensa que entendemos que en este hay que poner ya todos los recursos disponibles para ofrecer respuestas no entendemos que más

sintoma gehiegi ahalegin nahikorik egiten ez denaren seinale y la negociación presupuestaria el trámite presupuestario

pues precisamente eso más que nunca un mero trámite para alimentar un relato que el gobierno ha estado meses construyendo akordioak zabaltzeko

que tiene mayoría absoluta dice tener la voluntad de ampliar los acuerdos en torno a los presupuestos

pero rechaza la propuesta de euskal herria bildu sin siquiera sentarse a debatirla egia esan ez da berria euskal herria bilduk zentzu honetan

en fin es que es de risa estamos en un parlamento los presupuestos son una herramienta

llega a decirnos el gobierno literalmente que con indiferencia de que con nuestra propuesta pudiera mejorarse algunas políticas públicas planteadas en el proyecto de presupuestos

la dosis de realismo político económico suficiente para entender el papel de un partido político

y nos lo ha vuelto a decir hoy no el gobierno a gobernar y la oposición al parlamento zu entzunda norbaitek pentsa zezakeen epe ertain eta luzeko arlo

más que de necesidades de país y digan que no a nuestras propuestas

son viables son realizables y son necesarias eso es lo grave dena den

azkartzeko no nos ha explicado por qué no podemos utilizar parte del remanente presupuestario que tienen en la caja por ejemplo doscientos millónes proponíamos para rescatar a los sectores más afectados por la pandemia a los hosteleros comerciantes autónomos pymes por qué no se puede hacer si ya se hizo en la pandemia de verdad que

el gobierno también tiene que explicar a los y las residentes de las residencias y a sus familiares por qué abdica de sus funciones en planificación de servicios sociales

todo lo que está en sus manos para que en las residencias de araba y bizkaia se puedan ampliar los ratios y las condiciones

una revolución porque si tan orgullosas estamos de nuestro sistema de protección el gobierno no quiere hacer las modificaciones necesarias para adaptarlo y ofrecer una respuesta garantista y de derecho a todas esas personas que están sumidas en la mayor de las incertidumbres zergatik

que anda su representante en el congreso con propuestas rupturistas madrilen eskatzen duzuen elkarrizketa eta kontsentsua hemen

barneratzen joan beharko zenukete hori ere y claro el gobierno también nos tiene que explicar por qué en el marco del debate presupuestario no se puede hablar de fiscalidad

cuando se aprobaron los presupuestos con el partido popular para bajarles los impuestos

el ahora no toca o que esto está fuera del marco presupuestario pues ya no vale tenemos que hablar sobre quién y cómo se va a pagar la factura de esta crisis y tenemos que hablarlo sin demora y además

nos ha dejado muchos aprendizajes en este sentido

y este no es un problema de marco presupuestario ni siquiera un problema de viabilidad económica porque hemos demostrado que nuestras propuestas

el problema no es el marco presupuestario es el marco mental de este gobierno que tampoco quiere contar con la oposición en ningún espacio de decisión aurrekontu hauek

presidenta los socialistas vascos seguimos con interés las manifestaciones de euskal herria bildu en los días previos a la reunión de negociación de los presupuestos

reunión la exposición ante los medios de comunicación de su propuesta socioeconómica antes de dársela al gobierno y sus manifestaciones al descartarse el acuerdo por no ofrecer un margen real de negociación y del interés inicial

dicen que los trenes solo pasan una vez en la vida y no es verdad han pasado muchos muchos trenes para euskal herria bildu han visto que llegaban solo que

luego no se sabe cómo tienen la capacidad tremenda para intentar subirse

la cabina ni el control de mandos y como digo euskal herria bildu ha dejado escapar el tren el de ser un partido responsable que demuestra su capacidad de ser alternativa porque es capaz de comprometerse con el país cuando peor lo están pasando y cuando peor lo está pasando la sociedad vasca ustedes no

pero lo de ser un partido responsable con el país todavía les pilla muy lejos

porque ya disponemos de mayoría absoluta se desmoronan se caen como un castillo de naipes si las contrastamos con la realidad de lo ocurrido euskal herria bildu tuvo toda la legislatura pasada toda la undécima legislatura para influir para condicionar a un gobierno en minoría y aunque practicaron ustedes mucho eso de la arrogancia

dejaron pasar la oportunidad de influir y de condicionar

de falta de voluntad política por parte de los socialistas vascos incluso cuando nos vetaron para llegar a acuerdos porque según pasaron los ejercicios presupuestarios cambiaron de exposición y hubo disposición luz y taquígrafos para ese diálogo presupuestario se acuerdan

no llegó a buen puerto porque hubo sindicatos que les marcaron el paso y en la presente legislatura la vicelehendakari segunda se ha reunido con todos y cada uno de los grupos sin excepción y les ha explicado sus propuestas les ha abierto una puerta a participar aunque en esta ocasión no se hizo acompañar ni de cámaras ni de micrófonos para mostrar

bildu ha vuelto a priorizar sus intereses por presiones y por tacticismo frente a la suma de esfuerzos a la colaboración responsable

un instrumento útil para la sociedad la enmienda a la totalidad que han presentado no es más que un espejo de su contradicción permanente la descripción de la excepcionalidad del momento los socialistas vascos la podemos compartir sin reparo de hecho lo hemos venido manifestando desde la primera convocatoria electoral

que han sido literales de algunas manifestaciones hechas por la secretaria general de los socialistas vascos por idoia mendia frases exactamente y literales por eso compartimos también ese punto primero de su enmienda a la totalidad la necesidad de adoptar medidas urgentes y de futuro los socialistas vascos no solo la compartimos sino que las pusimos negro sobre blanco en nuestro programa electoral

y esas medidas urgentes para hoy y también las de mañana y las del futuro a corto y medio plazo

el programa de gobierno que ha firmado el partido socialista y el partido nacionalista vasco constituyen

el programa para la reactivación económica y el empleo dos mil veinte dos mil veinticuatro son estos presupuestos para dos mil veintiuno y es también

y son los planes estratégicos que ustedes conocen y los socialistas vascos nos hemos comprometido con cada una de estas medidas siguiendo el consejo que nos legó

hay que gestionar el presente y preparar el futuro y no deja de ser llamativo que el primer punto de la enmienda euskal herria bildu

haya sido el argumento esencial para apoyar los presupuestos de españa y de navarra y sirva también para rechazar los presupuestos de euskadi pero lo más llamativo aún

eso del estado emprendedor y que en los asuntos prioritarios de euskal herria bildu siempre los señalan y es el tema de la república vasca como solución a nuestros problemas está claro que será su objetivo político que será su programa electoral legítimo sí pero que no ha conseguido el apoyo necesario en las urnas y que ustedes lo plantean

en euskadi cuando está fuera del marco competencial del marco económico y político de esta euskadi real de hoy y sin embargo ese no ha sido para nada ni por asomo un argumento presupuestario empleado ni en españa ni en navarra para la aprobación de sus presupuestos para su apoyo a la aprobación de los presupuestos

como ha ocurrido con otras enmiendas de otros grupos parlamentarios que hemos visto en el día de hoy y en su caso para justificar la enmienda a la totalidad se remiten a lo que dijeron en dos mil veinte

habló de la excepcionalidad a la que nos podría llevar una pandemia y a la que ustedes citan en el primer apartado de su enmienda

cuando si algo tienen estos presupuestos en su literatura en sus cifras y en sus explicaciones y en todo lo que se refiere a su aplicación es una hoja de ruta clara

además de la implicación del gobierno de españa y la implicación de europa para sumarse y trabajar en las nuevas transformaciones que van a ser necesarias para afrontar la salida de esta pandemia

en nuestras estructuras económicas y además cohesionados socialmente

por dar lecciones una vez más y los socialistas vascos ante esta coyuntura sanitaria económica y social además de política hace ya muchos meses que optamos no por dar lecciones sino por dar soluciones nos comprometimos a ello y tras las elecciones reiteramos nuestro compromiso en el acuerdo de gobierno firmado entre partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra y dimos cuenta de nuestro compromiso

en aquella sesión de investidura refiriéndose a euskal herria bildu como referente del primer partido de la oposición

lo mejor y que salga pronto espero que tenga la capacidad de implicarse en acuerdos de país que no desperdicien el tiempo y que se impliquen sin complejos en políticas que sean

volvemos a lo mío o la nada o mis planteamientos o la nada

de que se le niega el pan y la sal que se le aplica el rodillo que se le aplica el autoritarismo

amagan mucho al principio pero nunca nunca rematan la jugada siempre se quedan en la frustración cuando toca lo importante cuando hay que dar el callo

nunca están ni se les espera pero bueno una más

que arrimar el hombro sumar fuerzas hacer política con mayúsculas en un momento y en unas circunstancias tan excepcionales como las que vivimos y tener además

una mayor certidumbre ante el futuro y una mayor fuerza en las propuestas porque si bien los números dan para sacar estos presupuestos adelante

sin duda iba a reforzar y a mejorar los presupuestos las soluciones planteadas por estos presupuestos podían ser sin duda mejoradas y enriquecidas y al fin y al cabo nadie tiene ni tenemos la verdad absoluta pero más allá de colores políticos lo que necesitábamos eran soluciones

soluciones y creemos que son al menos los socialistas vascos lo creemos

en gobernanza con la ley de cuerpos y escalas y la ley de empleo público con la planificación de la mejora de la calidad del empleo público con las negociaciones en las mesas sectoriales de educación y salud en igualdad justicia y políticas sociales respondiendo a los retos de los cuidados

aportando catorce millónes de euros al fondo de servicios sociales impulsando la digitalización del sistema vasco de servicios sociales estos presupuestos contemplan la atención a los sectores más afectados por las medidas sanitarias contra la covid diecinueve y con un fondo especial para las contingencias que no pudieran ser previstas

la de la resistencia y la de la reactivación económica en cuanto a su propuesta de desarrollar un marco legal que limite el precio de las viviendas de alquiler en euskadi que supera además el propio ámbito normativo de la ley presupuestaria y desde el departamento de planificación territorial vivienda y transporte

una movilización de todos los programas de todas las propuestas y las actuaciones en materia vivienda de alquiler dirigidos a establecer precios máximos que se sitúan en la debida escala por debajo de los establecidos por el mercado en cuanto a la renta de garantía de ingresos vuelven ustedes de forma recurrente a proponer una modificación de la ley a través de los presupuestos

focalizaron la negociación presupuestaria de dos mil diecinueve asunto que quedó pendiente con la proposición de ley de los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos de reforma cuya tramitación se paralizó a petición de bildu el mismo el día que se sometía

en junio de dos mil dieciocho bildu optó por no negociar las cuentas vascas para dos mil diecinueve y estando su prórroga presupuestaria desde el gobierno vasco expresamente una ley para incrementar las cuantías económicas de la renta de garantía de ingresos en dos mil diecinueve cuantías que se consolidaron e incrementaron en los presupuestos de dos mil veinte el gobierno vasco tiene el compromiso de plantear un nuevo proyecto de ley que llegará al parlamento vasco en el último cuatrimestre de este año

estos y cuantos asuntos los grupos parlamentarios consideren oportunos estos presupuestos no se van a devolver y continuarán su tramitación y saldrán con el mayor apoyo que las cuentas vascas han tenido en más de una década y en una coyuntura inédita como es la pandemia del covid que estamos padeciendo y son las primeras cuentas de una legislatura parlamentaria tras las elecciones autonómicas tras la decisión tomada por la ciudadanía vasca

respecto al depósito de su confianza en un momento de crisis sanitaria provocada por la covid diecinueve exigiéndonos esa ciudadanía esas urnas el resultado

ante esta decisión de la ciudadanía los socialistas vascos respondemos desde la responsabilidad y con sentido de país y lo hacemos de igual manera en los ayuntamientos

los socialistas respondemos alineando políticas institucionales y las soluciones que demandan en este momento euskadi y la ciudadanía vasca

hace planteamientos que superan ese marco presupuestario haciendo inasumibles de entrada una negociación presupuestaria incluso competencialmente

plantean ustedes asuntos sobre servicios sociales en los que la competencia es municipal y foral los socialistas vascos de nuevo por encima de cualquier otro cálculo nos comprometemos a fondo no queremos quedarnos en señalar con el dedo lo que falta por hacer

décimos cómo creemos que hay que actuar y nos comprometemos a resolverlo decía usted señora que había que ofrecer certezas lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo los socialistas vascos y en la ciudadanía vasca al menos tenemos una certeza que podremos contar con unos presupuestos para hacer frente a esta situación excepcional unos presupuestos y no será gracias a bildu una vez más pasa el tren otros tenemos que estar aquí comprometidos a utilizar

económica y social de euskadi con una hoja de ruta clara y sin ninguna distracción y sin generar

cuando hemos hablado de pobreza y desigualdad en gipuzkoa berak esaten du tiene que decir que gipuzkoa es uno de los territorios que tiene menor desigualdad en europa

pero también es verdad que la diputación foral de gipuzkoa tiene como uno de sus objetivos reducir la desigualdad ser un territorio con menos tasas de desigualdad y yo sí que creo que avanzar en la reducción de la desigualdad en euskadi es difícil cuando ya tienes tasas de desigualdad relativamente bajas

buruz ari zelako y eso yo creo que también hay que reconocerlo

o implica incidir en la fiscalidad bueno

porque si fuera un tema ideológico tendría que

no digo una similitud o una equivalencia cuando menos en los tres ámbitos pero es que los comportamientos son

diferentes por lo tanto no es ideología es estrategia que se aplica a este gobierno desde ese grupo parlamentario zergatik

hemen profunda reforma fiscal eta han nafarroan

eta berriro ere se reconoce que se mantienen

de cada parte sobre el grado de intensidad que tendrían que tener las eventuales modificaciones en el sistema fiscal navarro es el antecedente quinto del acuerdo

dado que no fue posible el año anterior se acuerda realizar

un estudio y otro informe sobre implantación de impuestos relacionados con la fiscalidad verde se mantienen posturas distintas en el fondo de la cuestión allí no hay ni una exigencia allí informe aquí condición eta argi dago que no es ideología

el requerimiento que se hace al gobierno cuantificado son cuatrocientos veintinueve millónes el acuerdo en navarra es de nueve coma cuatro millónes siete coma cinco que tienen

y después uno coma nueve para eso que criticabais el año pasado a podemos enmiendas clientelares

entonces aquí

y allí se ha cerrado con el cero coma diecinueve no hay equivalencia

y hubiera llegado el entendimiento el posible potencial acuerdo no ha sido posible pero voy a una cuestión más todavía más sangrante porque

y respeto su posición pero cuando se habla de las pensiones dignas etcétera etcétera y de las mínimas en navarra

qué recorrido ha tenido entonces seguimos también con los compromisos del veinte que no se han cumplido entonces dice

que el gobierno de navarra sin perjuicio de la normativa estatal aplicable en el plazo de seis meses realizará un estudio sobre la situación real de las cuantías de las pensiones de navarra

así mismo se le encomienda realizar una estimación de la afección presupuestaria que tendría

en primera instancia y a mil ochenta euros en la segunda fase estudio

o sea bildu viene a reconocer primero que la competencia en materia de pensiones corresponde al estado

que el gobierno navarro solo le compromete a que elabore un estudio de situación y una estimación económica sobre el impacto que tendría es una mera presunción que tendrían que complementar las pensiones más bajas referenciadas al smi

bien estas vaguedades e hipótesis en navarra ahí eh se convierten en imperativo en la comunidad autónoma se dice creo que es la

se dice que los ingresos mínimos garantizados a las personas pensionistas serán

es decir que a todos los perceptores de pensiones de la comunidad autónoma se les garantice cuando menos un ingreso mínimo equivalente a la cuantía del smi

lo que allí es un ruego para que se haga un estudio aquí es un imperativo allí informe aquí condición por lo tanto concluyo no sé si tendré tiempo después

no es ideología es estrategia es estrategia

además la ideología es a la carta a conveniencia

o política pero aquí no aquí se aplica otra estrategia y esa es

desnudar en mi segunda intervención esa estrategia porque la estrategia del no inamovible para el gobierno vasco y para el pnv es una constatación bien creo que es una estrategia equivocada la de la izquierda abertzale

pero también tengo una reflexión al respecto que espero

elkarrekin podemosi ez no es adecuado adelantar las respuestas antes de que se produzcan

en esa bilbainada que él mismo reconoció eta

presidenta señora kortajarena analizados los cuatro puntos que tiene su enmienda

la trataré luego tras además sus intervenciones yo debo decirle que

en el rechazo a la enmienda de totalidad que han presentado oficialmente y a esa propuesta

de la negociación presupuestaria mire los socialistas vascos no podemos estar más de acuerdo con el primer punto sobre la excepcionalidad del momento que además exige tomar medidas urgentes y de futuro y que además nos interpela a todos los partidos políticos lo he dicho varias veces a lo largo de esta mañana en el debate de las enmiendas de totalidad que han presentado los diferentes

y los socialistas vascos estamos tan de acuerdo que son estos los argumentos centrales que expusimos en nuestro programa electoral para las elecciones autonómicas de julio de hace algo más de seis meses y esos son precisamente además los ejes centrales del programa de gobierno

una hoja de ruta sus prioridades sus planes sus reformas estratégicas esas a las que nos hubiera gustado que se sumaran

en el segundo punto de su enmienda el estado emprendedor nosotros entendemos que es un legítimo objetivo de un partido o de cuantos partidos quieran pero

cuando ese no ha sido ningún argumento presentado ni en madrid ni en navarra para apoyar los presupuestos para dos mil veintiuno

no podemos estar más en desacuerdo señora kortajarena si hay algo evidente en estos presupuestos de euskadi para dos mil veintiuno desde la primera línea del proyecto de ley

inédita y excepcional y se ofrecen respuestas nuevas ante nuevos problemas sí nos llama la atención en cambio que reivindicando ustedes de forma

euskal herria bildu quien en defensa de su enmienda a la totalidad se remita

para dos mil veinte en el cuarto punto ese que llama una propuesta política integral para dar certezas no se pide la devolución de los presupuestos porque haya un presupuesto alternativo porque hubiesen trabajado ustedes un presupuesto alternativo sino porque

un diagnóstico de la gravedad de la situación que ya ha hecho precisamente el diagnóstico el propio gobierno vasco para elaborar estos presupuestos y que el partido socialista de euskadi comparte dicho diagnóstico y en lo relativo a los fondos europeos ya se ha realizado el debate más que numerosas veces hemos tenido hasta un pleno monográfico

y no se ha planteado en el de presupuestos porque como expresamente señala el proyecto todas las medidas planteadas enganchan con esos proyectos pero no dependen de esos fondos y son dos debates

en dos tiempos diferentes también el ámbito de la fiscalidad es compartido por el gobierno y por los grupos que apoyamos al gobierno y de ahí que tengamos el compromiso de hacer una reflexión sobre las reformas necesarias tras una evaluación de las reformas fiscales que llevamos a cabo

en esta cámara la tasa covid ese impuesto no es equiparable a otros impuestos extraordinarios que hemos tenido en el pasado porque hoy no nos enfrentamos a una crisis estructural sino que estamos ante una crisis provocada por una pandemia

podremos tener una recuperación de la economía y del empleo y por tanto también de los ingresos fiscales para euskal herria bildu esta situación excepcional requiere como solución que se devuelvan los presupuestos para dos mil veintiuno

con unos presupuestos prepandemia con unos presupuestos prorrogados

en el cuanto peor mejor a mí ya esto de que sea mejor un presupuesto pasado y no adaptado a una situación y encima en una coyuntura tan excepcional de verdad que me pone vamos de los nervios porque es que pensar que ustedes

o sea mejor el presupuesto dos mil veinte que no los presupuestos de dos mil veintiuno

es increíble y además es irresponsable y

añora ciertas actuaciones del gobierno vasco en cuestiones presupuestarias presupuestos del dos mil doce

van tarde que siempre van tarde es como si hubieran perdido van a contrapié es que lo acaba de decir mejor el presupuesto dos mil veinte pues hombre

un año después en fin andamos un poquito tarde y yo para terminar creo que el gobierno no está en ninguna burbuja señora kortajarena

y con sensibilidades todos tenemos familias amigos entorno en el que vivimos padeciendo esta pandemia todos pedimos cita telefónica al menos yo a los médicos todos tenemos hijos estudiando o muchos tenemos hijos estudiando todos tenemos amigos que están viviendo una situación en esos sectores

dura muy dura por lo tanto no estamos en ninguna burbuja no somos marcianos lo que sí presentamos son

se plantean soluciones y esas soluciones hoy las reales las que son tangibles esas son los presupuestos para dos mil veintiuno no quimeras que se están aquí planteando sin saber si se puede llegar

ocasión ya para finalizar lamento que los grupos parlamentarios no hayan hecho un ejercicio de responsabilidad para apoyar y reforzar estas cuentas

no hay mejor certeza para esta sociedad nada del pasado será mejor sino que vayamos adaptándonos a la situación que vamos teniendo gracias a los que

de hacienda y presupuestos han trabajado y a todo el gobierno que ha planteado unas acciones novedosas en muchos casos con la dificultad de no saber cuáles son

mucho ánimo en la implantación y en la gestión de estos presupuestos que hoy no van a ser devueltos gracias eskerrik asko corcuera andrea

eta estrategia por lo tanto

zerbait antzekoa esateko baina el por qué

cómo se explica uno el que con la aprobación de los presupuestos generales del estado se diga no solo que se va a tumbar al régimen sino que sentimos todos es innegable más cerca la república vasca con el voto de bildu a los presupuestos

comunidad internacional estará expectante estará valorando el hecho político planetario por el que bildu ha otorgado el voto a sánchez

pues no lo habéis justificando de esa manera lo habéis justificado de esa manera entonces

si con una aprobación de presupuestos se produce todo eso

sería fascinante cuál es la razón pues que bildu ha cambiado el campo de juego

pero está atendiendo sus urgencias propias no los intereses del país y para que nos entendamos todos es el denominado acuerdo

punto punto y ahí lo dejo

entrevista joan den astean le pregunta sobre presupuestos

no es renunciar a la utopía sino tomarla como inspiración para hacer proyectos viables de transformación con efectivos logros de libertad y de justicia social

el pensamiento utópico que no acepta el hecho de que sin la realidad dada

porque lo que hay que hacer no son reformas sino revolución es la mejor manera de garantizar la permanente frustración eta nik uste dut antzeko zerbait